la situación a la que el gobierno de españa sin el apoyo de su parlamento está llevando a cataluña incluso al propio pueblo español viola la carta de las naciones unidas y supone

incluido el pacto internacional de derechos civiles y políticos supone también una abolición de facto de la propia constitución española no solo viola y ataca

consagrado por el derecho internacional sino que ha abolido la libertad de expresar ideas políticas la de reunión la de asociación

por no hablar del derecho a la autonomía de la constitución española

de facto de un auténtico golpe de estado no solo el estado no ha sido capaz no está siendo capaz de proteger

de ciudadanos y ciudadanas a cientos de cargos públicos representantes de la ciudadanía de los grupos de extrema derecha ante los cuales se muestra absolutamente laxo

gertatu da espainiako gobernuaren aldetik no hacía falta ser

sino de defender derechos o libertades así hablaba la alcaldesa de barcelona ada colau el pasado domingo en la asamblea de cargos públicos

con la represión de los derechos fundamentales por parte del gobierno del partido popular

hemos llegado hasta aquí por un cúmulo incontable de despropósitos hay que remontarse hasta el estatut de dos mil seis aquel que fue cepillado en el congreso

aquella sentencia constitucional que estuvo fuera de todo tiempo pero sobre todo a la negativa del partido popular y del partido socialista a dar ninguna respuesta política a siete años de movilizaciones pacíficas y constantes de millónes de catalanes y catalanas las cosas no se han hecho bien es imposible no verlo

de la sociedad catalana y barcelona lo que estaba sucediendo eta baita ere

leku askotatik a por ellos hori entzuten ez gu ere ez gaude lasai horrekin qué despropósito más grande qué falta de cultura democrática qué absoluta irresponsabilidad de un gobierno que lo que está haciendo es azuzar tales cosas el gobierno del partido popular avergüenza

y por no tener la menor catadura democrática y darle igual

a una crisis de grandes proporciones con tal de seguir estando atornillados en el poder

y siendo cierto todo esto también lo es que hoy no se puede hablar del referéndum en relación con el uno de octubre no se puede hablar de referéndum

porque no interpela al conjunto de los catalanes a pesar de que va a ser una movilización ciudadana muy grande enorme y sobre todo pacífica una movilización de la ciudadanía que no quiere otra cosa que poder expresarse bere iritzia bakarrik eman nahi dute hiritar hauek

lurraldetasunaren inguruan edo edozein gaien inguruan esta ciudadanía tiene que tener

de poder expresar su voluntad al respecto del marco territorial porque no se trata únicamente de que puedan hacerlo tampoco se trata sobre todo de que lo hagan sin el riesgo de una fractura social y de conflicto ni dentro de cataluña ni de cataluña con el resto del estado

el fracaso de la política pero no por plantear cuestiones complejas sino por evidenciar que nuestras instituciones gobiernos y partidos no se quieren sentar ni a hablar ni dialogar ese es el fracaso

también es necesario afirmar que el estado del setenta y nueve el estado autonómico tuvo su sentido pero que ahora mismo está dando claras muestras de agotamiento

no se trata de cuestionar de dónde venimos o por qué se hicieron las cosas de esa manera se hicieron y punto y han rendido

pero cuarenta años después en algunos territorios existe entre la ciudadanía la inquietud por poder y por poder querer modificar ese marco y hay que abordarlo con naturalidad y con normalidad la constitución no es un dogma de fe ni es una biblia no puede serlo es un instrumento y es una herramienta

que hay que cambiarla a pesar de que te haya servido hasta ese momento

hay que repensar las normas y en esa labor desde elkarrekin podemos este sábado hemos hecho una propuesta concreta una propuesta que está pensada para euskadi

como por ejemplo a cataluña guk proposamen bat egin dugu

se trata de articular el derecho a decidir siguiendo la referencia de canadá con una ley de claridad para que existan cauces legales pactados y bilaterales

el que ha sido fiscal y magistrado emérito del tribunal supremo el señor martín pallín

también lo confirmaron otros expertos en derecho y constitucionalistas en la propia ponencia de autogobierno me atrevo a decir que si esta cámara quiere hacer de verdad algo útil

lo mejor que podría hacer es llegar a un acuerdo sobre los términos de ese pacto de claridad para instar al congreso de los diputados a aprobar una ley de estas características como se hizo en su momento en canadá y por qué hago esta afirmación pues sencillamente porque cuando uno lee la propuesta de hoy de euskal herria bildu la propuesta de euskal herria bildu pues se queda con la sensación de qué es un brindis al sol

de ver al partido nacionalista vasco convocar una manifestación contra el estado de excepción impuesto en cataluña por el mismo gobierno de rajoy del que ellos son

en la que por fin escuchamos que no se van a apoyar los presupuestos del partido popular para dos mil dieciocho en españa

y encima hoy sin ruborizarse votáis a favor de la propuesta de euskal herria bildu y también porque uno se queda perplejo al ver

porque el partido socialista lejos de mostrar alguna sensibilidad mayor con el recorte de libertades del partido popular y de la

lo que hace es callar y volver a callar es que hoy se vuelve a traer a esta cámara la situación en cataluña después de que la semana pasada

y en esa declaración criticábamos muy duramente la represión del partido popular y al mismo tiempo además reafirmábamos la exigencia de respeto a la voluntad de la ciudadanía catalana

que esto no iba de independencia sí o no sino que va de libertades y de derechos pues bien hoy el texto que se trae que trae bildu con toda la legitimidad del mundo de hecho

y lo hace con una finalidad muy clara que es que nos tengamos que posicionar en esta cuestión en clave de con unos o con otros de blanco o negro aquí sabemos bastante de eso como sabemos también

entre muchos partidos pero bien nosotros en esta dinámica no entramos

es hora de pasar de las dinámicas de choque de legitimidades y de choque de trenes que es el momento de política y de política de esperanza de abrir diálogo

de abrir caminos legales para que la ciudadanía catalana y vasca

pero no porque nos resulte indiferente sino porque queremos mostrar claramente que en este país en euskadi y también en cataluña y también en madrid y también en el resto del estado hay otro camino que hay soluciones y que el choque de trenes

y este camino pasa por cuatro principios claros el primero hay que romper una identificación el del gobierno del estado con el gobierno del partido popular no es lo mismo

los ayuntamiento del cambio el hamabostm las marchas de la dignidad

que también hay una perspectiva diferente y un camino diferente que se está abriendo en todo el estado el segundo principio que la estrategia del no de las amenazas

hoy se puede decir que la estrategia del partido popular no solo no ha resuelto la situación sino que la ha empeorado la ha complicado tercer principio que es necesario apostar a más democracia

es necesario más diálogo y acuerdos y hoy la negociación

que habrá un uno de octubre porque muchos ciudadanos y ciudadanas catalanas así lo quieren y da igual la policía

y que también habrá un dos de octubre un tres de octubre un cuatro de octubre

unas dinámicas en las que la mayoría de la ciudadanía vasca catalana y la ciudadanía española ni se siente cómoda ni se reconoce en esos extremos ni les considera útiles para resolver los problemas nosotros hoy nos abstenemos en la iniciativa de euskal herria bildu

que los problemas no se van a resolver eligiendo ni un lado ni otro se van a resolver construyendo un proyecto compartido que reconoce la pluralidad que reconoce las naciones

un proyecto construido desde el respeto desde la fraternidad y desde la convivencia

gracias presidenta bueno empezamos hoy este pleno por un cambio en el orden del día que ha propuesto bildu

las verdaderas prioridades de bildu se pone por delante las reclamaciones de los independentistas de otros temas que afectan a servicios públicos esenciales como la educación pero ese es el verdadero trasfondo que tiene la ideología que bildu

además hemos perdido las veces la cuenta de las veces que desde este parlamento se quiere mostrar por enésima vez la solidaridad con los independentistas catalanes y digo bien

hemos perdido la cuenta pero venimos a escuchar exactamente lo mismo las mismas posiciones las mismas diferencias cada jueves y cada dos viernes

y mi grupo no recuerda que en ninguna de todos esos pronunciamientos haya habido ni una sola solución señora iriarte ni una vemos una vez más que lo que nos trae es una propuesta no sé muy bien para que firmaron tres grupos la pasada semana una declaración a la que hacía referencia el señor martínez si en diez días tiene que volver a traerlo con un contenido y una orientación distinta si fueran coherentes con lo que ahí decían debiera haberles bastado ese pronunciamiento de nacionalistas dirigido a los nacionalistas

desnudo de ropajes lo que plantea el grupo proponente acordarse de una parte de los catalanes y los socialistas queremos acordarnos de todos de los nacionalistas y de los no nacionalistas que como mínimo son tan importantes en cataluña los unos como los otros porque son todos los que tienen en peligros sus derechos civiles y sociales porque el limbo jurídico señora uriarte es un riesgo para los derechos de todos

porque euskadi y cataluña son las dos sociedades plurales con sentimientos diferentes y que hemos compartido nuestra historia en el proyecto del conjunto de españa y porque los socialistas vascos y los de toda españa tenemos una preocupación real

de ese que ha faltado de ese que han aniquilado quienes en el pasado promovieron el agravio que sienten tantos catalanes y aquí sí independentistas y no independentistas de ese diálogo que no habido

los cauces de encuentro entre diferentes que identificaron durante mucho tiempo a la sociedad catalana de ese diálogo al que renunciaron quienes no querían en realidad el diálogo

eran escusa para impulsar un proceso unilateral e ilegal

no podemos evitar mirar a euskadi y lo que vemos es que acertamos quienes hace un año decidimos encauzar nuestras diferencias mediante un proyecto compartido para resolver problemas y no para crearlos y porque lo sabemos es por lo que firmamos en noviembre del año pasado sin ánimo de ser espejo de nadie

en lo que nos ha permitido ese cauce el diálogo el acuerdo la garantía de pluralidad y la ley en cataluña y en euskadi la propuesta que nos trae euskal herria bildu no contiene nada de eso ni diálogo porque lo que avala es un proceso que ha prescindido incluso de escuchar a los representantes parlamentarios catalanes que se oponen a esa vía ni acuerdo porque la vía como ellos proclaman es unilateral ni pluralidad porque excluye claramente

con la que no se solidariza porque sigue sin acordarse de tantos alcaldes que están siendo señalados de tantas casas del pueblo asaltadas de tantos militantes socialistas

ni ley tampoco porque digamos lo que digamos lo que se ha hecho está fuera de la legalidad podrá ser legítimo pero no es legal

quiero poner voz a algo que quizás no se ha escuchado suficientemente la voz de mis compañeros catalanes y voy a leer su posición que hacemos nuestra punto uno

es una cuestión no resuelta desde el año dos mil diez cuando el tribunal constitucional alteró el estatut votado por los catalanes en dos mil seis

un acuerdo razonable dos los gobiernos de cataluña y españa desde entonces han sido incapaces de establecer un diálogo serio para encarrilar esta cuestión

y la mayoría independentista que le da apoyo ha optado por una vía unilateral e ilegal es necesario recordar aquí que se han vulnerado ya y por este orden

esa vía unilateral e ilegal está condenada al fracaso y comporta la actuación de los poderes del estado para evitar la celebración de un referéndum que está considerado ilegal no por el partido socialista por los letrado del parlament de cataluña

y por la comisión de venecia del consejo de europa cinco nos mostramos contrarios al choque de trenes que otros minimizaban y seguimos defendiendo otro camino

un planteamiento que desgraciadamente no ha sido atendido y el choque de trenes del que advertíamos ha llegado seis el diálogo político sigue siendo la única vía que puede permitir salir de este callejón sin salida

gane en financiación y para que españa se transforme en un estado federal el pacto que proponemos debiera culminar en una reforma constitucional de carácter federal que fuera sometida

en la declaración de barcelona están recogidos los elementos esenciales de nuestra propuesta y valoramos positivamente el acuerdo impulsado en el congreso de los diputados de la creación de una comisión parlamentaria para abordar estas cuestiones séptimo en estos momentos llamamos a los gobiernos de cataluña y españa a detener una escalada

la solución al problema de la relación entre cataluña y el resto de españa no va a venir de la mano de los tribunales pero el respeto a la legalidad nos obliga a todos

no puede implicar en ningún caso limitar el debate político y los derechos consagrados en la constitución ocho es por todo ello que pedimos al gobierno de cataluña

de un proceso de diálogo y negociación al que estén convocadas todas las fuerzas políticas catalanas y españolas pedimos al gobierno de españa que dé una respuesta política a un problema político y que no pretenda que la única respuesta del estado a este problema la dé el poder judicial los presidentes puigdemont y rajoy deben hacer hoy lo que hace meses debieran haber hecho

nueve nos declaramos comprometidos a contribuir a encontrar una solución democrática y acordada a los problemas planteados y queremos emplazar todas las instituciones y partidos

llamamos a la serenidad y a la calma las instituciones democráticas tienen la obligación de encontrar una salida al conflicto abierto que vivimos y no deben trasladar a la ciudadanía la solución del problema los catalanes y catalanas tienen garantizados sus derechos y cataluña como país su autonomía

puede ponernos en peligro llamamos a la responsabilidad de los gobiernos de cataluña y españa para iniciar de forma inmediata el diálogo y la única vía reiteramos de solución todo esto es lo que una parte de cataluña está diciendo también y no oímos nunca que tengan en cuenta quienes quieran hacer de aquella comunidad una realidad uniforme que no es nos ha costado tanto conquistar espacios de libertad que garanticen la en euskadi que la queremos reivindicar también en cataluña

los socialistas nos ratificamos en que la apuesta que hemos hecho en euskadi por el acuerdo entre diferentes y el respeto a las normas es una de las mejores inversiones que se puede hacer
en la convivencia vasca muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

señores consejeros señora consejera señorías es verdad que

el último de los debates que sobre esta materia tengamos en este parlamento pero también es verdad

que cada semana que pasa se hace más difícil debatir sobre estas materias con serenidad

que las palabras cada vez son más absolutas que los pronunciamientos políticos cada vez dejan menos margen para que pueda existir un debate sereno y para que en cualquier caso podamos encontrar puntos de entendimiento y de esta manera lo hemos visto

absolutos golpe de estado estado de excepción vulneración de derechos humanos

traidores da igual la policía da igual la ley y con estos mimbres son con los que tenemos que hacer un cesto pero van ustedes complicando mucho la situación

legítima en política pero que con estos temas a nosotros nos parece una aberración

políticos que se aprovecha de que el pisuerga pasa por valladolid para desgastar al otro podemos con un discurso contra bildu porque juegan con un espacio también pretendido bildu contra el partido nacionalista vasco el partido nacionalista vasco veremos lo que dice es decir al final una melé

a través de la cual algunos se sienten extraordinariamente cómodos porque cuanto peor mejor

que es poco edificante y la realidad es que solo quien está dispuesto a saltarse la ley solo quien está dispuesto a cometer un delito es capaz de confundir la prevención de un delito

yo creo que su visión del derecho es un disparate y acabamos tener oportunidad de escucharlo porque la realidad subjetiva independientemente de aclaraciones que unos y otros hagamos es que usted nos pide pide a esta cámara

a un referéndum convocado los pasados seis y siete de septiembre a través de la aprobación de una ley de transitoriedad y una ley de referéndum para las cuales se saltaron todos y cada uno de los requisitos legales establecidos en el parlamento de cataluña y usted pide que mostremos nuestro apoyo

bildu nos trae aquí y nos convoca aquí para que mostremos respaldo y apoyo a una decisión del parlamento de cataluña que se saltó el procedimiento del parlament de catalunya a una decisión

lo han enumerado que contaba con la oposición del propio consell de garantías aprobado en el propio

que contaba con la oposición de los propios letrados del propio parlament

al procedimiento parlamentario a los grupos parlamentarios y a los derechos que asisten a los parlamentarios

nos piden adhesión y apoyo y esto es un verdadero disparate el planteamiento que nos hace en este caso eh bildu y todo ello además esos plenos del seis y siete de septiembre

que todos tuvimos oportunidad de ver a través de la televisión con una mayoría parlamentaria que representa el cuarenta y siete coma ocho por ciento del censo electoral en cataluña

cuarenta y siete coma ocho por ciento del censo electoral que no representa ni dos millónes del censo

a esta situación y ustedes nos piden que a esta vulneración de derechos

este parlamento le muestre el apoyo y la adhesión que le mostremos el respeto a esa vulneración de derechos civiles y políticos que asiste a los ciudadanos de cataluña y que fue violentado

por los independentistas en cataluña pero claro ni una palabra sobre esto la visión el objetivo la diana contra el gobierno del partido popular aprobaron la ley de transitoriedad y referéndum

con una mayoría que no les hubiera permitido ni tan siquiera reformar la ley electoral catalana no les permite aprobar

y convocan a los catalanes irresponsablemente a un referéndum de independencia y estos son los que nos hablan de democracia

y estos son los que nos hablan de voluntad de entendimiento y de acuerdo la realidad es que desde hace tiempo efectivamente pero con especial

y el estatuto de autonomía en cataluña suspender los derechos civiles que asisten a los ciudadanos catalanes

ofrecen es que ante esa vulneración absoluta el gobierno de un estado democrático y de derecho como es españa las instituciones de ese estado democrático y de derecho tendrían que haber hecho dejación de sus funciones

para ellos tengan decidida los independentistas en cataluña

política de primer orden pero en el segundo punto eh bildu nos plantea

es decir no cumplir con las resoluciones judiciales es decir dejar al arbitrio del gobierno de turno

con este precedente que se está estableciendo en cataluña quién decide

fundamental o no es de obligado cumplimiento para los poderes públicos

un parlamento con una mayoría de cuarenta y siete coma ocho por ciento dónde queda la confianza y la seguridad que otorga un estado de derecho el cumplimiento de la ley y de las normas que nos hemos dotado para que todos juguemos con las mismas reglas y con la misma capacidad dónde queda

un estado en el que son los poderes públicos los que deciden de manera arbitraria cuando una ley es aplicable cuándo los jueces deben de actuar cuándo los fiscales deben de actuar cuándo los magistrados tienen que pronunciarse es el político de turno esa es la sociedad que pretenden ustedes construir

que esta cámara que el gobierno de españa que la sociedad española que la propia sociedad catalana

de verdad que es lo que nos están planteando aquí y el tercer punto nos solicitan ustedes

que las instituciones vascas mantengan una actitud proactiva y de respeto con este referéndum

porque cada uno tiene el perfecto derecho y legitimidad porque estamos en un estado libre en un estado democrático y de derecho en el que cada cual puede manifestarse en los términos que quiera

conforme a ese sentimiento pero pretender enmarcar a las instituciones

y confianza y seguridad jurídica pretender enmarcarlas en un camino como este

una manifestación en euskadi una manifestación que pretende respaldar avalar y apoyar en las calles este disparate que les acabo de enumerar y ya tienen ustedes el apoyo el partido nacionalista vasco se suma a esa manifestación es un salto cualitativo es verdad enhorabuena a eh bildu han conseguido ustedes que el partido nacionalista vasco en esa senda peligrosa de incierto recorrido y desde luego

y esa voluntad de contagio que muchos tienen

tenga una expresión política y social en euskadi tenemos una inmensa responsabilidad quienes tenemos otro modelo de convivencia otro modelo de relacionarse otro respeto a las instituciones y ustedes

ustedes están aceptando el contagio están permitiendo que ese ejemplo que es el que ofrece en estos momentos la política en cataluña llegue a euskadi y nosotros les décimos especialmente al partido nacionalista vasco emplazamos especialmente al partido nacionalista vasco que no permitan que no den alas

y esa forma de entender la política esa manera de gestionar las instituciones y de entender el derecho y por lo tanto las normas de convivencia de las que nos hemos dotado

yo creo que euskadi nosotros defendemos que el entendimiento y el acuerdo es positivo no que sea positivo para los políticos o para las instituciones que también sino que es positivo y es razonable

ese acuerdo que nos permite oye dejarnos algún pelo en la gatera unos y otros

seguir avanzando la estabilidad institucional que permite la estabilidad política genera estabilidad social y desarrollo económico

cuando estamos superando la etapa más negra de la historia reciente de euskadi

jalonada de enfrentamientos jalonada de falta de comunicación de enfrentamiento social de familias que dejaban de hablarse de amigos que se separaban cuando lo estamos superando resulta que algunos pretenden que el ejemplo catalán que ya lo conocemos

es poco positivo poco edificante vuelva a euskadi votaremos que no a esta iniciativa obviamente y lo que

con especial singularidad al partido nacionalista vasco es que no permita que euskadi se contagie ni la política

de este ejemplo poco edificante que nos están dando los independentistas de cataluña muchas gracias eskerrik asko sémper jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

no se puede imponer hay que respetar

hay que respetar y se utilizan cauces que conducen inexorablemente al maltrato y a la humillación

no hay mejor respuesta que la de hacer un ejercicio de dignidad dignidad personal

dignidad política dignidad democrática y ese es el eje de esta materia o de esta cuestión yo decía antes en euskera

si no existe una igualdad de condiciones políticas en lo que se refiere

a derechos que asisten a identidades nacionales la apelación permanente que se hace al diálogo tiene un tope

de la soberanía en este caso española indivisible indisoluble y ofrece un diálogo a una comunidad política como cataluña

que se siente sujeto político y jurídico como un pueblo con derecho a decidir qué canal

que pueda fructificar si se impone desde la posición previa española la imposición de esa soberanía indisoluble

porque el diálogo dentro de la ley es lo que esa mayoría

conjugar el principio democrático resulta imposible porque si quiera conjugando el principio democrático que otorga legitimidad a unas determinadas posiciones políticas que democráticamente manifestada buscan un cauce de proyección y de concreción

conjugando el principio democrático todavía se pueden encontrar una vía de diálogo

pero si no se admite el principio democrático y se impone sin más como se pretende en cataluña

porque ya con toda las fuerzas de seguridad del estado hacia cataluña

recuerda aquella inscripción que tenían los cañones de los reyes

ultima ratio regum última razón de los reyes la fuerza

y la apelación al diálogo sino sino se desdobla esa posibilidad de principio democrático

posibilite los cambios legales correspondientes los marcos legales por sí mismo si no resuelven los problemas no valen para mucho tienen que servir para resolver los problemas y la adecuación tiene que ser de ese marco de ese marco legal o jurídico

por el pueblo de cataluña a través de los ciudadanos y ciudadanas el próximo domingo repito con una

y una papeleta en la mano vaya peligrosidad eskerrik asko egibar jauna

a ver miren señores del partido socialista y el partido popular el referéndum no es

porque en el estado español convocar un referéndum no es delito les guste más o menos no está en el código penal y este en concreto no ha sido ni tan siquiera declarado

no les digo que todos pero si al menos los más importantes que les recuerdo les recuerdo forman parte también de la legislación española

solo el uno del pacto internacional de derechos civiles y políticos en su adopción por españa lleva la firma

juan carlos de borbón y del entonces ministro de exteriores marcelino oreja

su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico social y cultural

cuénteme eso hablan ustedes desde defensa a la legalidad

no le voy a recordar la ley de la financiación de los partidos porque todos los tesoreros de su partido han sido procesados o imputados y mañana mismo creo que

que les obliga a presentar el proyecto de presupuestos antes del uno de octubre con lo cual ustedes se saltan todas las leyes quizás menos la de gravedad pero es que además incumplen sus sagrados textos incluso la constitución española cierran webs periódicos etcétera ustedes han regalado a la banca

millónes de euros de los contribuyentes de este estado unos novecientos euros por cada ciudadano del estado español

de legalidad su misión es tenerlo y dejarlo todo atado y bien atado lo dijo bien clarito aquí en bilbao

era irreversible y romper la unidad de españa era irreversible con lo cual

su orden de prioridades señor pastor cuando habla de sus compañeros se olvida de algunos de sus compañero porque alguno de sus compañeros en encuestas que hemos podido ver esta misma semana pues opinan que las actuaciones del fiscal y otras que han ocurrido esta semana no son desde luego de su agrado y son una gran mayoría en todo caso señor pastor su partido es responsable de todo esto que está pasando en la medida que zapatero dijo aquello de que iba a respetar lo que saliera del parlamento de cataluña luego le vimos a alfonso guerra diciendo que estaba encantado de cepillárselo

bueno de lado de un gobierno cuyo comportamiento es absolutamente antidemocrático

corren al registro del congreso español para pedir una comisión para estudiar la reforma

del cepillado digamos y siete años después de la sentencia del tribunal constitucional

qué me dice usted de los insultos que recibe la otra parte lander martínez

que cataluña ha llegado a la situación actual tras haber pedido dieciocho veces dieciocho veces un

un referéndum pactado porque el gobierno de españa no lo quiere lo ha dejado bien claro entonces pues no me diga a mí que hago brindis al sol yo lo que procuro es dejar a las claras lo que está ocurriendo ustedes trajeron una camiseta la semana pasada

a favor de los que están en contra de la democracia

que convoca gure esku dago no tiene ningún problema para votar a favor de esta moción

he empezado antes citando a ada colau y ahora entonces voy a empezar citando a manuela carmena que es alcaldesa de madrid pero que en este caso también

y creo que dice meridianamente claro además cómo cuál es la necesidad de utilizar la política cuál es la necesidad de utilizar

en un país y lo voy a citar no se puede

a la mitad de una sociedad el derecho penal no vale cuando se extiende a un colectivo social que en este caso además lo único que quiere hacer es expresarse las mayorías sociales no pueden reprimirse con el ministerio fiscal

este mismo señor sémper se lo dijera a su partido o se lo dijera a su gobierno

a los fiscales que la verdad es que en este caso no hay ninguna lección que dar con lo que estamos viendo estas semanas hoy vuelve a ponerse de manifiesto que

avanzar en las que falta un poquito de diálogo también ya lo he dicho antes no queremos entrar en esta dinámica y seguiremos reivindicando la necesidad de diálogo

vamos a seguir poniendo alternativas encima de la mesa como la del pacto de claridad un modelo de inspiración canadiense un modelo pactado bilateral

porque nosotros sí creemos que el estado es reformable porque como he dicho antes hay una diferencia entre el gobierno del estado y el gobierno del partido popular

el partido popular probablemente esté enrocado en esa posición y no vaya a cambiar pero el estado sí es reformable y queda claro cuando en este momento en el congreso a un tercio de la cámara que está a favor del derecho a decidir que está a favor de buscar vías democráticas que está a favor de avanzar en esas cuestiones y del diálogo el gobierno del partido popular

qué es lo que pasa que es un argumento muy bueno para su posición que es legítima que es la de

yo no le pido que renuncie a su ideal no le pido

no me pida usted no afirme usted que mi ideal es imposible yo sí creo

y creo que eso es posible por eso insistimos si esta cámara quiere hoy ser útil para ayudar a resolver los problemas de cataluña

para esta ley de claridad bilateral pactado y por supuesto con derecho a decidir por eso nos reafirmamos más si cabe en esta abstención en señalar de forma gráfica con el voto en mostrar con esta abstención

sino que hay matices dentro de esta cuestión hay una vía

de acuerdo de construir proyectos compartidos de fraternidad de solidaridad

porque creemos que en este momento cuando las libertades democráticas están

sufrimos vulneraciones de derecho no solo en cataluña sino en todo el estado

y eso no tiene que significar estar de acuerdo con el procés o incluso estar de acuerdo con cómo se hizo la tramitación de la ley del referéndum con la que no estamos de acuerdo pero bueno

sino que es necesario salir a la calle para mostrar que no vamos a permitir en ningún caso que se continúen con las vulneraciones de derechos y que efectivamente hace falta diálogo

falta vías democráticas para poder avanzar en la resolución de este conflicto eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

que lo decían cuando los jueces condenaban a terroristas de eta por haber cometido asesinatos también decían esas mismas palabras y por lo tanto

hacían ustedes en aquel otro momento y me llama mucho la atención que le preocupe a usted tanto

en estos momentos me sorprende ese fervor constitucional por parte de bildu pero usted sabe que lo que pasa en cataluña es otra cosa muy distinta

sabían perfectamente que estaban cometiendo una ilegalidad y sabían perfectamente

y lo que ocurre cuando se incumple la ley es que arrostra consecuencias a veces indeseables lo que se puede pedir es lo que nosotros pedimos es inteligencia y proporcionalidad a la hora de aplicar las medidas que establece la ley no que la ley no se cumpla ya sé que a ustedes no les gusta

que la democracia que son derechos son también reglas son también leyes y cuando las reglas las normas desaparecen la propia democracia se resiente aquí

y me va a permitir que discuta la mayor no existe en el derecho internacional no existe ningún derecho de secesión ni mucho menos unilateral

leído con todos los preceptos que establece la declaración de las naciones unidas

ni a cataluña no lo digo yo lo dice cualquier experto

y coger uno o dos artículos y olvidar los otros tres que también forman parte de la misma declaración de la onu en fin porque el referéndum como le decía antes no sé si se considerará legítimo por una parte de la sociedad catalana entiendo que sí desde luego lo que no es es legal y no lo dice el partido socialista

lo dicen los propios letrados del parlamento por lo tanto decir que no se comete una ilegalidad cuando la decisión se toma a sabiendas de que lo que se va adoptar allí es una decisión ilegal es

de los más gordos que he oído porque y por cierto una precisión respecto al cierre de los colegios

sobre el cierre o no de los colegios electorales en cataluña y yo estoy preocupado por lo que pasa en cataluña y usted me va a entender por qué porque los socialistas vascos sabemos mucho aquí en euskadi de lo que es que te señalen con el dedo

sino que te acaben incluso haciendo perder la vida por eso

porque afortunadamente en cataluña el terrorismo desapareció hace muchísimos años muchos más que aquí pero aparecen comportamientos antidemocráticos que me gustarían que fueran denunciados cuando se producen y eso no se da y

con una cita con una frase de jesús eguiguren aplicada a euskadi

pero tiene arreglo y como tiene arreglo y estamos convencidos de que lo tiene créame usted que nos vamos a dejar la piel para que ese arreglo sea posible eskerrik asko pastor jauna

permítame una cita para decir a los medios de comunicación y

lo que deja sin efecto el estatuto y lo que deja sin valor el ámbito jurídico que se ha construido hasta ahora hay que ser honestos y saber que se celebre

no tiene las garantías de vida iñigo urkullu lehendakaria

también esta reflexión lo que nos parece extraordinariamente sorprendente es que su grupo parlamentario vaya a votar precisamente lo que usted denunciaba lo que usted identificaba

democráticas es algo verdaderamente notable lo que el grupo parlamentario nacionalista va a hacer como es notable que estén ustedes

ya les van a llenar hasta las manifestaciones les otorgan el liderazgo les llenan las manifestaciones a pesar

poco edificante y del que deberíamos de huir pero el señor egibar nos da la clave

y dice la política es emoción el ser humano es emoción

pero a lo que nos toca a los políticos es templar las emociones es canalizar a través de la razón y de la ley esas emociones variadas y contrapuestas y desde la templanza buscar el entendimiento porque si nos gobiernan las emociones a lo largo de la historia tenemos y no voy a citar esos ejemplo a lo largo de la historia tenemos ejemplos desde luego

cuando se exalta la emoción por encima de la razón y por encima de la ley

lo que supone otorgar el liderazgo a eh bildu en esta materia consideren ustedes el incierto camino que se abre consideren ustedes lo que significa privar a las instituciones vascas

y que llena las calles somos una comunidad de derecho donde impera la razón y la ley porque lo contrario es el desconcierto es la imposibilidad de gobernanza sensata y razonable

cómo es posible que alguien pueda defender que un parlamento que la mayoría de un parlamento que representa al cuarenta y ocho por ciento del censo

millónes de catalanes se imponga sobre los cinco millónes de catalanes que componen ese censo y eso se pretenda vestir de gesto democrático

que sustenta además al gobierno no tiene ni la más mínima garantía democrática ni procedimental

ninguna podremos discutir de dónde venimos a dónde vamos

hace sus análisis probablemente haya muchos factores que hayan determinado que estemos donde estamos

durante muchas semanas y muchos meses pero lo que es una realidad objetiva es que lo que se pretende hacer el uno de octubre ha vulnerado cualquier procedimiento legal

ha vulnerado el propio reglamento del parlament de cataluña y ha vulnerado cualquier atisbo de procedimiento democrático señor

nosotros para terminar queremos volver a repetir lo que el

emplazamiento el ofrecimiento que les hemos hecho antes oiga

nosotros creemos que a euskadi le va razonablemente bien que el entendimiento que existe en esta cámara y en la política vasca

determinados escenarios profundamente negativos y poco edificantes política y socialmente

que estamos siendo capaces a través del entendimiento entre diferentes dotar de estabilidad política a esta comunidad a este país

través del entendimiento estamos siendo capaces también de generar estabilidad económica y social y que esto es un bien a preservar

reiterados al gobierno vasco para seguir tejiendo

comparten esta reflexión pero lo que sí es una realidad objetiva también al menos para quienes entendemos la política desde el pacto y desde el entendimiento

es una aberración política de todo orden y que no podemos permitir contagiar la política vasca y hoy con su respaldo

no solo les otorgan el liderazgo no solo les van a llenar

sino que además también van a huir como de la peste del entendimiento y del acuerdo y van a provocar que euskadi se contagie de lo que no deberíamos de contagiar y termino con una cita que me parece muy relevante también

en el contexto del año mil novecientos sesenta y dos en mississippi un gobernador

decidió con su poder político porque su comunidad le respaldaba

decidió saltarse la constitución de los estados unidos y permitir que las leyes racistas o que posiciones racistas siguieran imponiéndose e impedir que personas negras

en resumen de estar en desacuerdo con la ley

ningún hombre por muy prominente o poderoso que sea y ninguna turba

tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia si esta país llegará al punto

pudiera desafiar legalmente los mandamientos de nuestra corte y nuestra constitución entonces ninguna ley estaría libre de duda ningún juez estaría seguro de su mandato

estaría a salvo de sus vecinos muchas gracias eskerrik asko sémper jauna egibar jauna euzko abertzaleak zurea da hitza

preocupado por el pnv sus preocupaciones son las que

de la peste del acuerdo y del entendimiento nada de eso es verdad

y además en referencia a cataluña cuando apelaba además citaba al lehendakari sobre la referencia a las garantías que el proceso o el referéndum no tiene las debidas garantías efectivamente

se dedica a clausurar medios de comunicación quien persigue a los cargos públicos quien pretende inhabilitaciones políticas y personales quien anda a la búsqueda de las papeletas

las urnas quien obcecada y obsesivamente se dedica a eso

ese referéndum no tiene garantías mire señor semper eso tiene nombre propio en el diccionario de la lengua española eso es cinismo

yo estoy de acuerdo

el partido popular porque antes he citado yo

la del señor rajoy solicita y respuesta y observo y

que tiene rajoy que dice que él no puede disponer de la soberanía española

sí puede y pistas le han dado propuestas se le han trasladado al señor rajoy si puede desde la cámara

una consulta legal legal directamente

voluntad propia personal o colectiva resulta que se endosa la responsabilidad al resto a quien te está solicitando poder preguntar a tus conciudadanos y se le niega y claro la última vez también se lo dije

alfonso alonso pero son las palabras de rubio llorente no otra vez no es que

ya falleció el veintitrés de enero del dos mil dieciséis pero estuvo aquí en la comisión en la ponencia de autogobierno y cuando un

dice que si una minoría territorializada desea la independencia

el principio democrático impide oponer a esa voluntad obstáculos formales que puedan ser reeliminados por lo tanto

si la constitución lo impide habrá que reformarla dice

esto vendría en línea con el partido socialista pero antes de llegar a ese extremo

hay que averiguar la existencia y la solidez de esa supuesta voluntad y no hay otro camino que el del referéndum

o sea el referéndum se puede hacer previamente a lo que puede ser una modificación constitucional

de modalidades de referéndum y es posible que alguna iniciativa tengamos que presentar para explorar cual es la voluntad democrática también en el congreso de los diputados a este respecto porque eso sí es profundizar en la democracia y lo dice rubio llorente

de ser nacionalista y yo estaba apelando antes a los límites en los que nos estamos encontrando y es verdad que los sujetos políticos

constitucionalmente no reconocidos como tales sujetos políticos por la constitución española estamos jugando en un espacio político compartido

que niegan la existencia de esos sujetos políticos por lo tanto los límites al diálogo hay que ponerlos a la luz del principio democrático

se puede dialogar de todo sobre todo en la medida en que los proyectos políticos

defender y conseguir los sistemas tienen que garantizar la consecución de los proyectos políticos si la mayoría democrática

no lo queréis ver pero claro tapándote los ojos

y ver esa realidad la realidad de cataluña una cataluña que

uno de octubre va a ser diferente va a ser diferente se va a abrir una puerta

para la democracia también en el estado español y yo creo que va a ser una aportación positiva de ahí nuestra posición favorable

bai kaixo mila esker lehendakari andrea egun on guztioi hace casi un año que llegamos a este parlamento y lo hacíamos con iniciativas como la relativa a medidas de transparencia y prevención de la corrupción y del fenómeno de las puertas giratorias estamos contentos de que nuestra iniciativa saliera adelante en su día y pueda contribuir

a mejorar la futura ley de transparencia participación con medidas como la regulación de una agencia vasca de transparencia que funcione de forma autónoma e independiente

del personal cargo público de administración pública vasca así como la de adoptar medidas que fomenten la transparencia como instrumento eficaz de la prevención y solución de comportamientos vinculados a un uso incorrecto de los recursos públicos si bien es cierto que la enmienda transada con los grupos que sustentan al gobierno

un proyecto de ley imaginamos que ante la imposibilidad del gobierno de cumplir

quienes hayan traído a debate esta iniciativa en forma de proposición de ley desde elkarrekin podemos consideramos que una buena gobernanza debe promover la equidad la participación la transparencia la rendición de cuentas la responsabilidad y el respeto al estado de derecho

se deben a un método de trabajo basado en la consulta el diálogo la negociación y el acuerdo

en ningún modo puede quedar relegada a una buena gobernanza limitada a la elección de sus representantes al contrario debe tener la posibilidad

de participar de forma directa en la toma de decisiones políticas para ello precisa de un sistema que facilite el intercambio de información veraz entre administración

que se vea complementado con medidas dirigidas a la reactivación y al fortalecimiento de la sociedad civil por ello

impulsar una ley de transparencia y buen gobierno para el conjunto de las administraciones públicas vascas que permita poner en práctica una nueva cultura de gobierno que sitúe

hacer una apuesta firme por la utilización de los estándares open data datos abiertos para la gestión de toda la información institucional a fin de que esta pueda ser usada libremente por la ciudadanía crear de participación ciudadana y de consultas de ámbito vasco con la finalidad de extender e impulsar la creación de órganos y consejos abiertos a la participación ciudadana y regular mecanismos e instrumentos de participación directa potenciando el uso de las actualmente infrautilizadas consultas ciudadanas

general de cualquier forma desde elkarrekin podemos creemos en la necesidad urgente

y lo creemos porque hace tiempo que una parte de nuestra sociedad dejó de creer en su clase política y sus demandas elevan el nivel de exigencia mucho más allá de retóricas y claman por una política radicalmente distinta que

pero no basta con abrir un portal de transparencia o de actuaciones parciales de lo que se trata es de asumir que una nueva cultura política se abre paso y es necesario potenciarla todas las medidas que desarrollemos en este sentido revertirán en una mejor y más sólida democracia y fortalecer la democracia en el sentido de hacerla más transparente y participativa

y la propia convivencia no debemos olvidar que el actual sistema de garantía de ingresos hoy vigente es deudor de la iniciativa legislativa popular y no de ningún gobierno

de responder a las necesidades de la mayoría social con un funcionamiento eficaz transparente participativo y ejemplar

la posibilidad y la responsabilidad de participar de forma directa en la toma de decisiones políticas y en las cuestiones que afecten a su vida diaria es la sociedad quien con sus decisiones conforma la base de la democracia y esto solo puede darse cuando los gobiernos y gobernantes son capaces
de mirar a los ojos directamente a la ciudadanía porque no tienen nada que ocultar mila esker eskerrik asko macazaga andrea

hacer una intervención en el turno a favor de esta ley porque creo que el empujón

es una tarea pendiente de esta cámara pero que fundamentalmente

regular el modelo de rendición de cuentas porque la transparencia está ya en el día a día del gobierno vasco desde hace varios años porque queremos ofrecer servicios a la ciudadanía no solo desde la responsabilidad y la vocación social

para seguir el rastro de los euros que los vascos y vascas dejan en manos de nuestras administraciones en forma de impuestos la transparencia debe ser una marca de agua de todas las políticas públicas que se hagan desde el conjunto de las instituciones y con ese afán es con el que hemos planteado la proposición de ley de transparencia y participación ciudadana

todo aquello que se comenzó impulsando desde el gobierno socialista y que seguimos impulsando años después desde la oposición y que se ha incorporado al compromiso conjunto que tenemos suscrito sobre la acción de gobierno para esta legislatura que queremos reforzar con un amplio consenso y bueno señora macazaga quiero agradecer al grupo podemos

de esta proposición de ley porque queremos que todo el mundo participe sume pero sobre todo que valore positivamente el esfuerzo que se ha hecho por ambos grupos

de ley porque en su momento ya conseguimos dar pasos en esta cámara aprobando la ley de incompatibilidades y como también aspiramos a completar

porque son tres normas que son complementarias entre sí creemos que el texto que planteamos responde a una ambiciosa propuesta de transparencia radical porque cambia el eje

no es por tanto una mera reordenación de prácticas que ya se habían puesto en marcha con anterioridad esta ley pretende contribuir sobre todo a superar miedos y dejar atrás

los datos de que disponen las administraciones públicas la información ya es el poder de los ciudadanos pero no es solo una cuestión de rendirse a la evidencia para los socialistas esto es una cuestión de profunda convicción política hace dos legislaturas en euskadi se inició una experiencia desconocida sin ninguna ley que obligara a ello el gobierno de patxi lópez aprobó el primer código ético

irekia servía y sigue sirviendo para dar cauce a la participación ciudadana y también se publicaron las condiciones para la contratación pública

para su posible reutilización pública por parte del conjunto de la ciudadanía es lo que se conoce como open data y con todo ello en dos mil doce logró la máxima puntuación de transparencia internacional y esas prácticas fueron asumidas por el gobierno después pero quedaba algo más quedaba saldar de esa exposición de herramientas de transparencia a la radicalidad que me refería al inicio de mi intervención y lo que queremos hacer es que sea un concepto nuevo

activa esto supone una obligación para los sujetos concernidos por esta ley la obligación de hacer pública por propia iniciativa de manera periódica y actualizada

que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública

es la propia administración quien va a ofrecer y va a evaluar y la va a explicar y lo va a hacer con un lenguaje claro y entendible ya no queda a decisión de ningún gobierno

actualizarlo y evaluarlo como tampoco habrá excusas para otras instancias directa o indirectamente dependientes de lo público esta norma afectará además a los tres niveles institucionales

la modernización de las administraciones públicas y a todas las instancias que interactúan con ellas hablamos por ejemplo de los centros educativos y de salud concertados

igualmente también se prevé la publicación de todas las subvenciones que se otorguen y también las de los grupos de interés que deberán estar inscritos en un registro específico

régimen sancionador de forma que la garantía de esos derechos ciudadanos a la información y a la participación

nuestra vocación en definitiva es que se pueda seguir el rastro de cada euro que los ciudadanos dejen en manos de las administraciones a través de sus impuestos hasta que ese vuelve al propio ciudadano sea en forma de prestación de servicios públicos de ayudas diversas o de becas el único límite que debemos tener en cuenta es el de la protección de datos y estoy convencida de que será posible tramitar esta ley

proponer la ley reguladora de cargos públicos y conflictos de intereses y hoy conseguimos sortear las dudas y reticencias de otros grupos hoy nadie cuestiona aquella ley y eso esperamos con este texto los socialistas lo planteamos

no se entiende sin responsabilidad pero sobre todo sin rendición de cuentas gracias

sí muy brevemente señora presidenta muchas gracias después de varios intentos digamos fallidos a la hora de fundamentalmente a lo largo de la pasada legislatura en la que hubo una importante participación de los grupos parlamentarios aportando a través de enmiendas bueno a través de enmiendas intentando mejorar

presenta a través de otra fórmula de tramitación parlamentaria

que buena parte del debate en torno al contenido material de la ley de transparencia y buen gobierno hoy ha sido debatido y hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones y parece que hay

de contemplar el presente texto legislativo nosotros compartimos y lo hemos dicho en muchas ocasiones que es importante y que es fundamental que tengamos una ley de transparencia

hacia sus instituciones y que esta ley igual que otras todas

no cumplir porque dice no sé qué cosas extrañas o que no gusta a determinados políticos

es más eficacia en la gestión y creemos también que es más control y más participación y por lo tanto mayor legitimidad para las instituciones

a través de enmiendas y con nuestra participación en la tramitación de la ley porque entendemos que el texto tal y como está presentado y conocemos la voluntad del gobierno va a obtener seguro a buen seguro un consenso muy amplio

guztiz desegokiak izan direlako gure ustez sí nos hemos abstenido nos hemos abstenido porque aun defendiendo que se trata de un tema fundamental para tener una mejor administración no se puede tratar de esta manera digamos tan poco elegante podríamos decir porque no está de más recordar que el gobierno

transparencia participación ciudadana y buen gobierno en su programa de la décimoprimera legislatura es decir de esta legislatura y por lo tanto en esas estábamos

a su calendario legislativo pero miren por dónde nos encontramos hoy aquí con una proposición con una proposición de ley presentada por el pnv y el partido socialista de euskadi es decir que en vez de tener entre manos una propuesta de ley presentada por el gobierno con todos sus informes pertinentes y cumpliendo todos los trámites estipulados tenemos una proposición de ley que fusila

la propuesta del gobierno de la legislatura pasada es decir que hoy tenemos aquí un documento fruto

de la administración es decir de funcionarios públicos presentada como trabajo de dos grupos parlamentarios y para rizar más el rizo hoy se atreven a presentar aquí como propio que contiene enmiendas presentadas por otros grupos de esta cámara al documento que el gobierno presentó la legislatura pasada porque para mi sorpresa no he tardado ni cinco minutos en encontrar y reconocer frases enteros escritos por mí misma en este documento presentado por el pnv y el partido socialista y señorías estas no son formas estas no son formas de un buen gestor quizás hayan sido las prisas por traer leyes a este parlamento y así dar imagen de actividad legislativa pero así no señorías partido nacionalista vasco y partido socialista así no por la puerta de atrás no y el colmo del despropósito es que justamente lo han hecho con la ley de transparencia y participación ciudadana toman un atajo todos los pasos que un proyecto de ley debe cumplir para traer al parlamento la ley que debe establecer los principios generales sobre transparencia evaluación pública

edo eutsi beste biekin ez bada en la legislatura anterior nuestro grupo parlamentario euzko abertzaleak estuvo estrechamente comprometido con todo lo relacionado con la transparencia

y lo hemos convertido junto con el grupo socialista en un tema central de nuestro acuerdo de gobierno para esta legislatura asimismo

que en sede parlamentaria en el primer pleno ordinario de esta legislatura el pasado quince de diciembre

y socialistas vascos traer a esta cámara un texto articulado para que pudiera ser debatido lo antes posible en este foro y así

a la aprobación de un cuerpo legal específico que obligara a las administraciones a reforzar el principio de transparencia con la ciudadanía y promoviera a su vez herramientas eficaces para la participación ciudadana en los asuntos públicos esperamos que a la tercera sea la vencida

que alumbre una nueva cultura administrativa creo que es posible

de este texto base se han tenido en cuenta las aportaciones como lo ha dicho la señora pinedo

queremos que esta proposición de ley de transparencia y participación ciudadana se convierta pronto en una realidad ciudadana

la vista atrás y señalar culpables o responsables de que no dispongamos a día de hoy de una norma básica que atienda en nuestra comunidad a los requerimientos públicos y a la transparencia la experiencia acumulada anterior legislatura ha servido para que tomando como referencia el proyecto de ley que el gobierno vasco tramitó en la cámara dispongamos hoy de un texto articulado y trabajado y con la amplitud suficiente

como para permitir que todos los grupos hagan las aportaciones que consideren oportunas y contribuyan así a mejorar el producto final lehen esan bezala oinarri dira

voy a intentar exponer las razones por las que nuestro grupo parlamentario registró

antes del verano y de también algunos debates acalorados que hubo

respecto al turismo nuestro grupo registró una iniciativa cuyo objetivo era

a abordar y a presentar también en este parlamento una propuesta

abierta porque no les señalábamos demasiadas cosas o prácticamente nada al gobierno nuestra iniciativa una propuesta para que se abordase la conocida como tasa turística

en la sociedad que ha sido debatida en los ayuntamientos a los que más afectaría esta cuestión y que ha sido también debatida

en esta cámara decidimos dejarla para después del verano la iniciativa y nosotros pensábamos después de escuchar declaraciones de responsables políticos de diferentes partidos y especialmente de los partidos que sustentan el gobierno del partido nacionalista vasco y el partido socialista euskadi

facilidad porque entendíamos por lo que estábamos escuchando a través de estos responsables políticos que más o menos

íbamos avanzado hacia una opinión mayoritaria favorable a establecer ya

de esta tasa turística con ese espíritu inicié las conversaciones para llegar a un acuerdo

sobre la iniciativa que traíamos a esta cámara y la verdad es que sí que me llevé

con lo que finalmente ha pasado y es que no hay un acuerdo mayoritario que solo hemos podido transaccional nuestra iniciativa con el grupo eh bildu a quien agradezco la disposición y finalmente con ellos

la transacción y no hemos podido llegar a un acuerdo con los demás grupos fundamentalmente con el partido nacionalista vasco y con el partido socialista de euskadi porque el partido popular ya sabíamos

el grupo más reacio a nuestra iniciativa así lo habían expresado también en algunos ayuntamientos pero no ha podido ser bueno nosotros creemos que en este caso

valentía para ir un poco más allá y se quedan en

conversaciones que se estudie que se vea la posibilidad o no de iniciar o de plantear esta tasa turística

porque hemos escuchado a responsables del partido nacionalista vasco como el alcalde de san sebastián expresarse de manera favorable a la implantación de la tasa turística y a responsables del partido socialista de euskadi como el teniente alcalde también del ayuntamiento de donostia

de la tasa turística e incluso al consejero señor retortillo le hemos

declaraciones favorables a la posibilidad de la tasa turística es verdad que

que se tiene que plantear esta cuestión pero en cualquier caso favorables incluso allá por el mes de abril el señor retortillo

iniciado algún tipo de contacto con agentes del sector y que no encontraba opiniones

de la tasa turística y porque además tenemos los posicionamientos de importantes ayuntamientos no solo el de donostia también el de zarautz ayuntamientos

posicionamientos no solo favorables sino que han solicitado esos plenos

incluso con unanimidad han solicitado a esta cámara que se traiga este debate y que se inste al gobierno a establecer la tasa turística por eso con esos mimbres finalmente nos extraña nos extrañaba que el partido socialista se haya quedado a medio camino

y hayan tendido más a firma una transacción con el partido nacionalista vasco y con el partido popular que en nuestra opinión

a las posiciones de reserva del partido popular que lo que planteaba es que bueno que se abra el debate hablemos con todos los agentes y ya veremos si la tasa

claro que esta tasa o llamada tasa turística si se hace bien y en nuestra iniciativa dejaba las manos muy abiertas al gobierno si se hace bien es una

y por lo tanto no entendemos que el partido socialista y el partido nacionalista vasco

y con reservas nosotros creemos que eso supone una

creemos que responde a una falta de valentía no sabemos

qué se debe y lo que constatamos desde luego es que la posición que traen hoy

comprobable algunos de sus compañeros con importantes responsabilidad de gobierno en por ejemplo en el ayuntamiento de donostia

nosotros vamos a seguir defendiendo que euskadi necesita una tasa turística que es una buena propuesta que es una buena medida que luego hay que definirla

y nosotros estábamos abiertos a que el gobierno

y traerla a esta cámara pero entendemos que es buena

nosotros entendíamos que esto ya debía haber sido recogido en la ley de turismo que se aprobó la pasada legislatura apurando los tiempos justo antes de acabar la legislatura así lo entendieron también incluso el ayuntamiento de san sebastián que así

del año dos mil dieciséis justo antes de que se aprobara la ley pidió que se recogiera en la ley esta cuestión finalmente no pudo ser nosotros no pretendíamos venir aquí a hablar del pasado ni a reprochar que se incluyera o no se incluyera en aquella ley que además se aprobó por amplia mayoría de esta cámara

así también se lo dije al señor casanova a no hacer ninguna referencia a la ley de turismo de hecho en la transacción que finalmente presentamos no hacemos ninguna referencia a la ley de turismo y por lo tanto es también una propuesta abierta a cuál sea el método que el gobierno considere más oportuno para traer a esta cámara

la tasa turística una tasa turística que no es ninguna ocurrencia que es un debate viejo que está aplicada

esta tasa turística que los que no la tienen que es una tendencia en alza en el mundo entero y por empezar por nuestro entorno en francia

y con resultados positivos reconocidos así por diferentes grupos políticos también en aquel lugar en italia también en roma en venecia en diferentes ciudades se aplica esta tasa y también en el estado español la tenemos en cataluña

hace algunos años por lo tanto

herramienta útil en primer lugar pensamos que es una herramienta útil porque contrario a las reservas que pueda tener alguien

turística no va a repercutir negativamente en el turismo y en la afluencia de turismo que podamos tener en euskadi o a la que podamos aspirar en euskadi esto mismo lo ha reconocido el señor retortillo

en más de una ocasión es una herramienta útil sobre todo y esto viene recogido también en la transacción

que presentamos con el grupo de eh bildu porque nos permite recaudar un dinero que sirve para sufragar unos gastos extras que genera el turismo en algunas de nuestras ciudades porque entendemos

que sean los turistas los que paguen el total de estos gastos en nuestras ciudades pero entendemos que es injusto que seamos las vecinas y los vecinos de los barrios los que tengamos que soportar

de los gastos que supone este turismo un turismo que yo no voy a cuestionar un turismo que si se gestiona bien es positivo porque puede generar

si eso se gestiona bien pero que genera también unos gastos y unos gastos que hay que sufragar gastos varios de luz de limpieza mantenimiento diario etcétera

y pagarlas las y los vecinos y porque además puede permitir si también lo queremos así

en mejorar nuestra actividad turística y allí

pero lo permitiría y finalmente también porque esta ley

a los municipios no les impone nada al contrario es en este momento cuando municipios que quieren aplicar esta tasa y que así lo han expresado como

no pueden hacerlo y por eso nos están pidiendo a este parlamento que instemos al gobierno vasco

de que puedan aplicarlo el partido socialista y el partido nacionalista vasco finalmente con el partido popular se han quedado en pedir que se inicie la interlocución con diferentes agentes entre ellos eudel nosotros como pueden ver ustedes en nuestra

recogemos esto nosotros no nos oponemos en absoluto a ello al contrario nos parece absolutamente necesario que antes de que el gobierno traiga esa propuesta se hable con eudel

instituciones que sean necesario pero nos parecía importante que dicho esto se recoja también que es necesario que el gobierno presente

la iniciativa yo me había ofrecido también y así se lo trasladé ayer a la señora corcuera a eliminar

en nuestra iniciativa no queríamos que esto fuera una cuestión de que en tres meses no da tiempo

entonces no nos importaba el plazo e incluso yo estaba dispuesto

pero estábamos dispuestos porque queríamos que esto saliera adelante porque entendíamos que es una petición mayoritaria

de euskadi una iniciativa por lo tanto que dejaba

muy grande al gobierno una iniciativa

sino que le daba mayor libertad y una iniciativa que permitía se hacían bien aprovechar el turismo para que las vecinas y los vecinos no tengamos que soportar un gasto extra por lo tanto entendíamos que es una buena iniciativa entendemos que

apoyada por los diferentes grupos yo no me voy a atrever a decir exactamente por qué no la apoyan supongo

socialista de euskadi pero lo que sí está claro es que una parte de ellos sí están de acuerdo con lo que traemos hoy a esta cámara y así lo han expresado por unanimidad

de darle una vuelta yo voy a pedir el voto para nuestra transacción

que no salga adelante y que nos quedemos a medio camino y también voy a esperar a ver si es verdad que el gobierno inicia eso que ustedes le van a pedir porque también hemos tenido tiempo hasta aquí el señor retortillo ha tenido tiempo

algunos contactos ya hizo para abordar este tema y tener más o menos una visión de lo que los agentes tanto eudel como los agentes del turismo o las instituciones

dando vueltas y seguir analizando más y más y más si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el establecimiento de una tasa turística mi grupo está de acuerdo mi grupo cuando esto se debata y se aborde

concreto y quizás tengamos diferencias con otros grupos pero lo que lamentamos es que hoy perdamos la oportunidad de pedirle al gobierno que presente ya una iniciativa

buenos días señores consejeros señorías efectivamente elkarrekin podemos nos presenta una iniciativa en que insta a modificar la ley de turismo

al objeto de incluir la posibilidad de que los ayuntamientos del país vasco de la comunidad autónoma puedan establecer una tasa turística para las pernoctaciones que se realicen en los municipios yo aquí le preguntaría una cosa cómo se incluye

la posibilidad no lo sé igual usted tiene una explicación habla de algunos ayuntamientos la ley va a ser para algunos ayuntamientos para qué ámbito municipal estamos hablando señorías de la tasa turística pero está mal llamada

llamemos a las cosas por su nombre impuesto en españa este impuesto por estancias turísticas

el ámbito de aplicación es toda la comunidad autónoma todo su territorio no hay posibilidad de que un ayuntamiento elija aplicarla o no lo recaudado se destina a un fondo para el fomento del turismo para financiar políticas turísticas para mejorar la competitividad

y una parte importante se reparte por un lado a entidades locales por otro lado a barcelona como ciudad y otra al valle de arán

la implantación de este impuesto lo llaman ecotasa

no es tasa es ecotasa pero sigue siendo un impuesto lo llamen como lo llamen este impuesto tiene carácter

para estancias se crea el fondo pero no hay reparto para las entidades locales solo lo gestiona

la comunidad autónoma por lo tanto el destino no va a ir a los ayuntamientos

lo va a gestionar desde ese fondo para inversiones de preservación y modernización del medio natural marino rural y agrario para el fomento

tienen que redimensionar para atender al turista esto

para hacerla más competitiva pero no para los ayuntamientos por lo tanto ajustemos lo que queremos y cómo lo queremos hacer

se ha rechazado en poner ningún tipo de impuesto turístico en canarias hubo un debate se rechazó se vuelve parece

canario en valencia se está abriendo el debate y en europa hay ciudades que lo tienen parís

y otros sí nosotros no compartimos la necesidad de este impuesto turístico

aumentar el porcentaje de pernoctaciones por turista los impuestos raramente generan simpatía entre los ciudadanos y levanta en armas al sector que en definitiva es quien tiene que poner la cara para poner la tasa usted me decía su

en su conclusión con quién se han reunido a quién han consultado porque yo también soy turista

de opinar por lo tanto ustedes que son los reyes de la participación o eso nos han vendido en veinticuatro horas hemos debatido me ha tocado debatir dos iniciativas del grupo elkarrekin podemos

en la que se han comido la participación la han dejado al lado y las dos iniciativas suponen un impuesto para ciudadanos ayer hablábamos de la recogida y retorno de envases que encarece la recogida por lo tanto lo que yo pago por basuras me va a subir

pero no han hecho participación de nadie no han consultado con nadie y hoy debatimos esto que también supone

nosotros tenemos muy claro que este impuesto tiene que ser en algún caso con consenso pero desde luego hoy por hoy este impuesto creemos que puede generar

efectos negativos al sector hotelero y también al empleo y al comercio no estamos en condiciones de perder un solo empleo ni de generar dinámicas negativas

los turistas salimos con un presupuesto salimos con un presupuesto a pasar un periodo de tiempo y si yo lo dejo en la tasa

si lo dejo en la tasa igual no me tomo una caña si lo dejo en la tasa

por lo tanto vamos a valorar cual es el efecto positivo que usted dice y cuál es el efecto negativo nosotros creemos que esta tasa este impuesto es una merma de capacidad de gasto del turista que claramente va a dejar de gastarlo en otros servicios

que esto primero hay que hacer una consulta y unas reuniones con el sector para saber cuál es su criterio

nos parecía oportuno la mesa del turismo bueno lo ampliamos a eudel fantástico vamos a hablar con el sector y que ellos nos cuenten cual es su criterio igual estamos equivocados no lo sé igual estamos equivocados

pero es que aquí ustedes no dan la oportunidad de que hable y opine el sector eso lo hacíamos algunos que somos ya antiguos clásicos

ustedes los nuevos en un año se han olvidado de aquellos principios que supuestamente

yo creo que ustedes tratan de imponer nosotros creemos y pensamos que es mucho mejor mejorar la gestión y hay capacidad de mejora en la gestión

lo que usted ha puesto aquí de manifiesto y ese problema que se genera en algunos ayuntamientos eso no es un problema de los turistas es un problema de financiación local

que tenemos que repensar cómo se financian las entidades locales pensamos pero no a costa del turista

hay que ser mucho más concreto en este tema porque usted dice posibilidades algunos no si problemas de financiación local tienen todos los ayuntamientos los que tienen turismo

exploremos también eso y que hay posibilidad de mejora en la gestión y no tener que recurrir a un nuevo impuesto pues también por lo tanto

de imponer nuevos impuestos y como le decía dónde han dejado ustedes la participación eso que parece que era imprescindible en nuestra vida

podemos debatir yo no me niego a debatir pero yo quiero datos

y cuáles son los problemas de financiación local que tiene cada ayuntamiento el que tiene turismo y el que no porque por qué vamos a solucionarle

al ayuntamiento de san sebastián los problemas de financiación local que tenga esa tasa va a ir a la comunidad autónoma del país vasco y no

o una ley será para todo el arco del territorio del país vasco de la comunidad autónoma de euskadi

nosotros desde luego y ya lo hemos expresado en esta cámara en distintas ocasiones apostamos por una reforma fiscal que baje la presión impositiva por lo tanto lejos

muy lejos porque necesitamos bajar la presión fiscal a las familias y a las empresas para que hagan más turismo entre otras cosas por ejemplo

votaremos a favor de aumentar esas cargas impositivas y además es que los argumentos que se nos han esgrimido aquí pues es que no justifican eso por lo tanto nosotros hemos hecho una enmienda de transacción que nos parece que es por donde se debe empezar

qué opinan y consultar con el sector hotelero que al final va a ser el cobrador de la tasa

y el afectado también o no no lo sé que nos lo digan

egun on guztioi me ha enternecido señora lópez de ocariz su ferviente llamamiento a la participación ciudadana

claro que hay que consultar vamos a consultar y proponemos consultar

y a todo aquel que tenga algo que decir por supuesto que aquí se plantea una propuesta abierta en la transaccional a la que hemos llegado con elkarrekin podemos

dando la oportunidad de que aquellos municipios que quieran hacerlo es decir siempre desde la

puedan hacerlo que es una realidad que a día de hoy no existe ya veo también que en su partido a la hora de hacer ruido sobre el turismo

problemas reales del turismo que son estos y no la moción que ustedes traen esta tarde pues hacen mutis por el foro y están en otro sitio yo creo que es un reflejo real de lo que a ustedes

tasa bat en cataluña por ejemplo la tasa oscila entre los cero coma cuarenta y cinco céntimos y los dos coma veinticinco euros por noche en baleares

también está implantado en importantes países de europa y además es una cuestión que no va asociada a ciudades que espantan el turismo sino precisamente a ciudades que son muy atractivas para el turismo como roma como parís como ámsterdam como viena berlín o bruselas hay dos modalidades o bien una cantidad fija por noche o bien establecer un porcentaje del gasto total y como decía esto es algo que está funcionando en el estado español está funcionando y está funcionando en otros lugares como ciudades de estados unidos japón marruecos etcétera etcétera inportantea da jakitea dagoeneko martxan dagoela eta dagoeneko

que a los ayuntamientos les supone el aumento de población que

un fondo de compensación turística que podría apoyar a aquellos ayuntamientos y a aquellos municipios que no tienen tanta afluencia turística y que no tienen de alguna forma

por ejemplo tenemos ahora en la zona de las encartaciones el karpin

que es el principal atractivo del valle de carranza en términos turísticos junto a las cuevas de pozalagua y que está en una situación de apuros económicos este fondo podría

o cualquier otra cosa que para un ayuntamiento pequeño pueda ser difícil sostener económicamente pero que realmente pudiera ser un atractivo turístico que desde este fondo se podría acudir a financiar y por eso no entendemos la actitud de hoy no entendemos la actitud de hoy que es una propuesta que si quitamos la literatura se queda reducida absolutamente a la nada

es que van a hablar de una cosa van a preguntar no ponen plazos no se comprometen a nada

esta propuesta que ha aprobado este bloque conservador o que va a aprobar y nada es exactamente lo mismo

es que en este gobierno en materia de turismo como en otras tantas si de algo carece es de capacidad de liderazgo y este gobierno llega tarde a los debates

comparecencia del consejero de turismo en esta cámara para dar cuenta

sobre la tasa turística si estaba dispuesto a implantarla o no pero es que no es algo que yo haya inventado esto es algo que venía todavía

una opinión formada me parece realmente sorprendente y más sorprendente cuando a través de diferentes manifestaciones públicas la anterior consejera del ramo

cuando el propio consejero ha dicho que bueno con condiciones pero sí podría estar a favor de la tasa cuando ayuntamientos con mayoría de los grupos que respaldan al gobierno han pedido

sorprendente que no se quiera llegar a ningún compromiso y repito no se trata de obligar a los ayuntamientos a que implanten la tasa

que les permita hacerlo y no es una hipótesis el decir que hay ayuntamientos que lo desean porque ya expresamente a través de sus plenos han votado y nos han pedido que lo hagamos y por tanto aunque solo sean algunos y algunos no pequeños si hablamos del mundo del turismo en euskal herria como son donostia y zarautz aunque solo sean esos hay que tener en cuenta esa consideración y otros ayuntamientos quizás entiendan que esa no es la vía

con una propuesta cerrada y por eso la transaccional lo que hace es efectivamente articular el debate pero lo que querríamos ponerle a ese debate es un referente

se pueda poner en aquellos sitios que la quieran poner y lamentablemente como decía

un turismo sostenible que están ahí en el alero algún periódico ha calculado que podrían ser como mínimo siete millónes de euros pero estamos seguros de que sin forzar demasiado la mano podría ser mucho más y por tanto entendemos que a un gobierno lo que le corresponde

ganar tiempo no eludir sus responsabilidades y decir que efectivamente si se quiere tasa turística se va a poder poner se va a poder poner que no se va a imponer

el compañero de elkarrekin podemos por razones que se nos escapan pues nuevamente se esconde la cabeza en un agujero y se rehúye liderar el país

y la lástima o lo lamentable es que crea que eso va calando y no cala señor casanova usted desde ayer con más ímpetu hoy con algo menos sigue repitiendo que falta liderazgo en el gobierno vasco en materia de turismo y eso no es verdad y yo puedo ser tan tozuda como usted repitiendo que eso

en su iniciativa original esa modificación legal para posibilitar a los ayuntamientos vascos el establecimiento de una tasa turística por pernoctaciones que se realizasen en sus municipios y en las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios había dos puntos de vista diferentes la enmienda que planteaba en este caso bildu de la necesidad y la imperiosa de implantar esa tasa turística no de manera digamos imponiendo la tasa decidiendo que sí o sí se pone la tasa y luego estaban una serie de enmiendas por parte dos en concreto tanto por parte del partido socialista de euskadi como del pnv

venían a indicar era la necesidad previa de comprobar la oportunidad o no

apelando en primer lugar a la opinión del sector más afectado que era el de los ayuntamientos para conocer su opinión para hacer con ellos una reflexión seria importante porque esto tiene consecuencias no es una cuestión voluntaria como dice el señor casanova la tasa podrá ser de voluntaria digamos

y puedo pretender que el gobierno me implante una tasa pero

los ayuntamientos de al lado porque esa implantación mía por parte de un ayuntamiento tiene también sus consecuencias en el ayuntamiento colindante en el ayuntamiento de al lado y eso es lo que

o no les interesa ver en este caso la enmienda que presentábamos nosotros pretendía instar al gobierno a iniciar oficialmente una interlocución con eudel para conocer y abordar en el seno donde se abordan las políticas generales municipales que afectan por tanto a los municipios cuál es su planteamiento ante la posibilidad de establecer normativamente una tasa o un impuesto turístico cuya aplicación será la del ámbito municipal

lo que queremos es que se contraste en el ámbito donde tiene lugar la adopción de decisiones por parte de los propios ayuntamientos que ya son mayores de edad y que por lo tanto es un ejercicio de autonomía también municipal un ejercicio del principio

municipal y en la enmienda de transacción que hemos presentado lo que pretendemos es que el gobierno vasco analice con las administraciones vascas que también las hay porque la diputación foral de gipuzkoa también ha dicho que le parece interesante la implantación de esta tasa no así otras diputaciones

de euskadi y por lo tanto pretendemos que con esas administraciones vascas y también con los agentes del sector turístico se plantee la necesidad o no de implantar esa tasa turística

en caso de ser oportuno ese establecimiento claro que hay una diferencia no solamente de modulación del procedimiento señor hernández yo le agradezco el esfuerzo porque así me lo comentó ayer y hoy lo ha expuesto en esta tribuna el hecho de

un procedimiento pero no es un problema solo de procedimientos

en seis o en nueve es que también está es importante las formas

que los ayuntamientos ejerzan su derecho a hablar de esta cuestión entre todos conociendo cuales son los pros para todos y los contras para todos y esa es la cuestión el respeto al principio institucional que tienen los municipios a través además

el derecho que tienen a manifestarse porque les afecta a ellos y les afecta al sector turístico en cada uno

y tienen que saber que por mucha voluntad que tenga el ayuntamiento de san sebastián de implantar una tasa turística que por cierto

se tuvo que aprobar y que parece ser que alguno de nosotros debió de boicotear con animadversión tuvo tiempo de plantear esa cuestión la tasa turística pero hete aquí que no se plantea un mes después y como digo el ayuntamiento de san sebastián puede estar efectivamente

de entender que la implantación de esa tasa turística es interesante es importante

pero puede ser que el ayuntamiento vecino entienda que es un problema si él no la implanta es un problema el hecho de que

a implantarla él ese es el problema ese es el problema y por eso tienen que decidir ellos no nosotros a ver si nos atenemos a que cada administración y cada institución tiene sus propios derechos y el derecho a ejercerlos

es un problema de prudencia yo entiendo que ustedes y que bildu pues estando en la oposición puedan tranquilamente plantear el sí porque sí pero nosotros no tenemos la responsabilidad

si la tasa turística está bien planteada y tiene una buena implantación será positiva para los ayuntamientos sí claro y si no es así

un buen instrumento para el ejercicio de las acciones municipales de un ayuntamiento

qué ocurre y por eso no es un tema de valentía es un tema de prudencia y de hacer una reflexión

cuestión para nosotros la participación del sector además de eudel y de los ayuntamientos la participación del sector turístico es clave en esto no podemos olvidarlos porque aquí hay muchas cosas que decidir también decía el señor casanova hablaba

y efectivamente son múltiples esas cuestiones y cada una de ellas tiene afecciones cada una de ellas si ponemos a

esto no es un juego esto no es me voy a poner la medalla de que he logrado implantar la tasa turística en euskadi

al cielo que no que se trata de que sea efectiva tiene que ser un impuesto efectivo y para eso necesitamos del concurso de todos los ayuntamientos y de todo

mire había entre los pronunciamientos favorables estaba también el del comité de expertos para la reforma de la financiación de las entidades

de municipios y provincias en julio de este mismo año hace escasamente dos meses este comité de expertos proponía por ejemplo crear

hoteleras planteaba también una armonización de la normativa para que no hubiese discrepancias entre administrativas al no ser un tributo

y es en ese marco en el que también los socialistas nos encontramos y se lo digo con sinceridad cómodos

abierto y tiene que ser un debate entre todos porque el beneficio será para todos y porque francamente si no acertamos en la determinación

perderemos todos vamos a perder todos la ciudadanía también porque la ciudadanía también vive

del sector turístico y perderemos todos no será una cuestión de que los privados del sector

y lo público está por otros derroteros no no se trata de eso y efectivamente llevamos mucho tiempo hablando de esta cuestión

los socialistas planteamos también que se implantaran

y le planteábamos cuál era nuestro análisis porque habíamos oído determinadas declaraciones que venían hablar que se estaba estudiando el tema de la tasa

tuvimos una comparecencia de una consultora que nos explicó también cuál era su punto de vista respecto a la tasa bueno pues desde dos mil trece mire usted si ha llovido rato largo además

que a día de hoy todavía no está implantado una tasa algún problema tendrá algún problema tendrá

para tratar estas cuestiones solo que los temas hay que tomarlos con prudencia y por lo tanto si es un tema de financiación habrá que exponerlo pero entre todos como lo digo en conjunto

entre su enmienda y la nuestra la última además la de transacción

añade el plazo de bildu que están muy obsesionados siempre con los plazos esto tiene que ser para ayer mejor que para mañana evidentemente nosotros también y ojala ojala esa reflexión

en un breve plazo de tiempo yo no confío en ello porque cada ayuntamiento mirará para su casa y no va a ser un debate fácil de exponer entre todos va a tener sus complicaciones pero desde luego el de hoy

para que entre todos y todas podamos tomar una decisión al respecto que estoy segura que será la mejor para todos y para todas eskerrik asko corcuera andrea

la situación al mismo tiempo y esa es otra de las características que tenemos en euskadi la situación digo del turismo en euskadi es muy heterogénea

que sí tienen turismo mientras que otros por decirlo así no tienen apenas

la actividad turística y es por eso una de las razones por las que nosotros defendemos su implantación a nivel local y que los ayuntamientos sean los que en plena libertad puedan decidir el imponer o establecer esa tasa o no pensamos y quizá

creo yo matizaciones nosotros lo que propugnamos con nuestra enmienda es hacer una reflexión igual es no sé

pero nosotros sí que pensamos que es importante hacer la reflexión y llevar a cabo la reflexión

lo explicaba muy bien y hay que hacer esa reflexión evidentemente con eudel y con el propio sector y bueno tenemos que seguir adelante y tenemos que

esa vía nosotros pensamos también que la recaudación de lo que pueda ser

tiene que ser para sufragar los gastos extra que origina el turismo y la actividad turística pues en los ámbitos de la seguridad del tráfico la limpieza

ahora bien yo estoy totalmente de acuerdo y alguno lo ha citado con el consejero retortillo a mediados de julio avisaba que nadie tenga la tentación de utilizar esta tasa como un freno al turismo porque eso no lo va a conseguir el propio

muy pequeñas y lo suficientemente pequeñas como para no disuadir a los visitantes como nos ocurre a nosotros por cierto digo

puntos o destinos turísticos de euskadi y efectivamente hay experiencias

por lo tanto nuestra posición es clara somos favorables

la implantación de la tasa turística aunque ello debe ser primero reflexionado con los municipios y con el sector y esa es un poco nuestra posición

base municipal y tiene además una fundamentación aparte de todo lo que se ha dicho

si ustedes se fijan por ejemplo en bruselas que alberga las principales instituciones de la unión europea más una sede de la otan existe una población flotante muy importante

que no está empadronada en bruselas capital que por tanto no paga allí sus impuestos con lo cual con los impuestos de los empadronados en bruselas

ofrecer una serie de servicios a una población muchísimo mayor

de los que están empadronados por tanto yo creo que se pueda asemejar perfectamente a eso y

evidentemente una recaudación que insisto tiene que ir a gastos de limpieza seguridad tráfico conservación e impulso del patrimonio cultural histórico y artístico y esa es nuestra posición eskerrik asko

a cabo que una ley de turismo incluya la posibilidad de que los ayuntamientos

yo descargaba camiones pero se lo voy a preguntar a sus compañeros en el ayuntamiento de donostia que aprobaron una moción llevada por mis compañeros de equo y ezker anitza izquierda unida irabazi en la que decía literalmente

insta al gobierno municipal a que realice cuantas gestiones considere oportunas para que la futura ley de turismo incluya la posibilidad de que los ayuntamientos de la comunidad autónoma puedan establecer una tasa turística

el teléfono de sus compañeras en el ayuntamiento y que ellos me dirán cómo se hace bueno en cualquier caso nosotros no traíamos una proposición de ley traíamos

precisamente abierta para que no hubiera pegas para que no pudiera haber excusas a la hora de llegar a un acuerdo sobre la necesidad de instar al gobierno a abordar ya este tema que como también se ha dicho por todos los grupos es un tema viejo parece ser que aunque sea un tema viejo hay que seguir reflexionando sobre el tema alguien incluso nos dice que tiene que haber más participación o que quizás debamos convocar

asamblea popular para debatir de este tema no lo sé y se ha dicho por varios intervinientes que se lleva hablando de este tema mucho tiempo dos mil trece

sea mejor o peor porque todavía no se haya resuelto esta cuestión pero lo que sí voy a decir es que si tanto tiempo llevan hablando de esta cuestión cómo es posible que no se haya avanzado nada y que

a traer una propuesta una iniciativa además abierta

que se hagan todas las interlocuciones con los agentes que haga falta públicos privados con eudel con los ayuntamientos etcétera pues

que no porque hay que establecer previamente esa interlocución nuestra enmienda recoge que se haga esa interlocución y si hubiera habido voluntad de acuerdo

y por lo tanto habría tiempo de sobra para establecer esa interlocución con garantías

y no hacer finalmente una mala propuesta no es cierto que se plantease

de que se incluyese la ley de turismo después se hizo

con tiempo y no compartimos lo de que si se aprueba algunos ayuntamientos se puedan ver perjudicados no obstante en nuestra iniciativa ya se recoge que se abre con eudel y como llevan debatiendo tiempo con este tema

que aquellos ayuntamientos que consideren que se les puede perjudicar también tenían tiempo de haberse expresado pero desde luego que se pueden expresar nosotros si usted me dice por qué se van a ver perjudicados pues bueno nosotros desde luego no lo vemos y usted me plantea qué pasa si luego se hace mal que hay que hacer las cosas bien pues si es que nuestra iniciativa

que insta al gobierno a que haga las cosas dejándole las manos absolutamente libres bueno ustedes están en el gobierno digo yo que usted al menos considerará que van a hacer las cosas bien por lo tanto no sé usted

en lo que yo propongo que usted no comparte pero ese riesgo no existe

yo registré esta iniciativa en mayo y no hemos salido en prensa ni una sola vez con esta cuestión a mí esta es una cuestión que para colgarme medallas yo con esto no o sea con otra cosa pero con esto no

creemos que realmente la tasa turística es una buena iniciativa y porque lo hemos visto en otros sitios de europa como se ha dicho aquí donde llevan años con ella y donde los resultados son positivos por eso la traemos yo no he hablado nada de público privado en esta ocasión

sí es una cosa que a mí me importa mucho pero no he hablado nada de público privado miren nuestra iniciativa es una iniciativa que se ha visto el partido nacionalista vasco comparte

cuando ha explicado lo que defiende el partido nacionalista vasco sobre la tasa turística es que es lo que traemos en nuestra iniciativa lo que traemos en nuestra iniciativa con un plazo de tres meses que yo ya he dicho que para nosotros no era ningún problema quitar ese plazo pero es esa iniciativa

pero hoy aquí no se han atrevido a dar el paso yo creo que más pronto que tarde espero que volvamos a tener este debate y espero que más pronto que tarde

porque es buena y veremos entonces por qué y a qué se debieron

era una iniciativa que no ataba las manos al gobierno que no era una iniciativa para arremeter

que están pidiendo importantes ayuntamientos que no va a repercutir negativamente en otros ayuntamientos y que va a ser buena para el conjunto de la sociedad y va en esa línea de que efectivamente determinados gastos extras que son reales que es verdad donostia no es la capital del mundo del turismo en cuanto a masificación yo no he venido a decir eso pero genera unos gastos

o aquel municipio que lo considere oportuno porque no impone

españa tiene diecisiete comunidades autónomas y este impuesto se está aplicando en dos comunidades autónomas

esto no es una aplicación mayoritaria es más bien minoritaria

turístico más de setenta y cinco millónes de turistas en el año dos mil dieciséis este año será un diez un doce por ciento por encima

casi mayoritaria por las bondades que ustedes nos anuncian

otras comunidades autónomas que tienen volúmenes de turismo

no tienen el debate encima de la mesa valencia lo tiene ahora canarias ya dijo que no en su momento y ahora parece que alguien lo quiere volver a retomar

es que esto hay que valorarlo entre administraciones y entre el sector y ahí es donde estamos señor casanova ya sé que a usted

que el partido popular el grupo popular llegue a acuerdos ya nos lo ha dicho en otras ocasiones y no me extraña porque tantos años intentando eliminarnos y que hoy todavía estemos aquí defendiendo los derechos de los ciudadanos vascos

bastante eso parece que es lo que demuestra su actitud nada más y muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

y yo porque no yo voy a tratar de dar argumentos dar argumentos que demuestren usted también pero

en los dos escúcheme y luego lo valorará y a ver si es capaz de rebatir

de la política turística en este país el gobierno se ha puesto de perfil el gobierno va a remolque el gobierno ha escondido la cabeza como el avestruz en los pisos turísticos tuvo que ser una moción de eh bildu y en la tasa turística una propuesta de elkarrekin podemos y qué ha hecho el gobierno en este tiempo

abocado a dar cuentas cuando son otros grupos los que traen debates candentes a esta cámara con propuestas hablaba antes el señor uribe etxebarria del caso de bruselas como evidentemente es una ciudad que tiene una población flotante enorme y es precisamente la ciudad no sé si del mundo pero de europa que tiene la tasa más alta precisamente por la desproporción

y es verdad que yo creo que existe un consenso aquí escuchando a todos los grupos en el sentido de que efectivamente el turismo y esa población flotante genera unos gastos extras sobre unos servicios

una necesidad de esta financiación extra y por otro lado como sabemos hay ciudades y pueblos de este país que no tienen esa presencia tan alta de turistas

pero que quizás no tengan los recursos suficientes para poner en valor determinados elementos patrimoniales arquitectónicos o naturales que realmente podrían valer para reforzar su oferta turística por tanto tenemos la necesidad

y a ustedes no se les ha ido a hacer una propuesta cerrada una propuesta impositiva una propuesta que buscara no pactar o ponerles en un aprieto si el señor hernández ya lo ha comentado si han tratado de negociar al parecer absolutamente flexibles

lo que diga el gobierno lo que diga los partidos que sostengan el gobierno para que de aquí salga eso sí un compromiso con la

porque lo que no es una hipótesis es que ya hay ayuntamientos que las están pidiendo

y luego a partir del debate que se diera con todos los agentes sociales por supuesto

la fórmula más adecuada y tienen ustedes encima de la mesa una oferta abierta la han rechazado dice que nos obsesionamos con los plazos hombre es que una propuesta para ser propuesta tiene que tener dos cosas por lo menos unos objetivos y un contenido y me dice no es que no hay que poner plazos y bueno y el objetivo es debatir si yo después de escucharla a usted señora corcuera

ciudades del mundo la tasa turística pensaría que realmente es imposible que hay que darle tantas vueltas y revueltas y me dice que desde dos mil trece con un argumento a favor de su posición desde dos mil trece ya hemos dado vueltas

en dos mil veinticinco seguiremos dándole vueltas entonces lo que queríamos es que se fijará la voluntad de permitir a los ayuntamientos que ya lo están solicitando no es una hipótesis repito es la realidad la voluntad de que esos ayuntamientos pudieran implantar la tasa turística

para que esa implantación consiguiera el máximo consenso y recogiera

que están llamados a participar tampoco entiendo en qué afecta la tasa a los ayuntamientos vecinos supongo que nos lo aclarará porque si efectivamente fuera suprimir algún tipo de impuesto o tasa que permitiera hacer una oferta

un ayuntamiento que pone una tasa teóricamente lo que hace es estar en peor condiciones luego vemos que empíricamente lo que se demuestra es que casi esa tasa

no supone un elemento de disuasión y ya digo es que no estamos hablando de un experimento estamos hablando

y cuya eficacia está en todos los lugares del mundo yo no entiendo que cuando

se quieran la anterior consejera también dijo que estaba a favor

o que hay determinados lobbies de presión que a ustedes no les dejan

tiene su lógica pero que algunos estén presionando y condicionando la acción de los poderes públicos más allá de lo que le corresponde como aportación de patronal de un sector determinado

sí gracias presidenta señor casanova

y ninguna presión para que le vaya quedando claro yo por el resto no hablo pero por mí y por mi partido y por el consejero

vamos a ver su mantra falta capacidad de liderazgo

comercio y consumo pues mire que no que no porque si toda su argumentación son los dos aspectos fundamentales que para usted le parece en el tema del turismo que son

tranquilo entonces dos asuntos uno de ellos lo han solucionado ustedes mentira

el de las viviendas turísticas mentira y no es la moción de bildu la que salva el tema de las viviendas turísticas y sonría pero es verdad es verdad porque usted tiene culpa y tiene eso que llaman pecado porque usted tan ferviente defensor de la famosa ley de turismo

que planteó una serie de comparecencias de muchos sectores del ámbito del turismo no se hubiera percatado de cuál era el problema de las viviendas turísticas

lo puede ver gracias a que vinieron aquí dos plataformas que llevaban el tema de vivienda turísticas y apartamentos turísticos

no me diga que no porque es verdad entonces claro primer argumento su moción obedecía al plan que el propio consejero le planteó

sí señor casanova es que yo ya sé que le duele pero le estoy dando mis argumentos usted ha dado lo suyos ha dicho que eran los mejores bueno pues los míos sí que son superiores a los suyos mucho mejor

y el propio consejero le planteó un plan para las viviendas turísticas que usted se saltó a la torera

cuando planteó su moción exclusivamente le importaba el censo de viviendas turísticas ilegales exclusivamente

y era que efectivamente el plan del consejero se veía reflejado en esa transacción

que lo ha traído podemos eso para empezar o sea que no venga aquí de salvapatrias porque tampoco es así

oiga la tasa turística no es el elemento fundamental para la cuestión turística seguro que no convendrá conmigo en que no es uno de los elementos sustanciales puede ser un elemento más de recaudación de los ayuntamientos pero desde luego no va a ser ni la piedra filosofal que van encontrar todos los ayuntamientos para la recaudación porque no depende de ese impuesto seguro

no vienen de ahí vienen impuestos como el ibi por ejemplo de ahí vienen

municipales y por lo tanto esta tasa es una mínima cuestión importante porque supone un plus y me decía el señor hernández por qué no se ha puesto antes porque llevan ustedes debatiendo desde el dos mil trece oiga le vuelvo a repetir porque había una crisis una crisis económica

turística que suponía un impuesto más podía ser desincentivador

esa era la cuestión y esa es la piedra angular de todo el tema no es porque seamos una banda de negados y negadas porque yo no lo creo pero eso es lo que ocurría y de ahí que no se hubiera podido plantear a los ayuntamientos que bastante crisis vivían con el hecho de vamos a implantar una tasa a ver quién puede acogerse a ella pero es verdad que la situación en la coyuntura económica ha cambiado se ha modificado

puede ser primero más serena segundo podremos determinar si así lo consideran los mayores afectados que son los propios ayuntamientos si así lo consideran

se podrá establecer la tasa y también el sector privado tendrá que decir algo y tendrá que verse involucrado en este sistema porque cómo se va a recaudar si es que en muchos sitios hablaban no no es que está muy claro aquí se recauda por pernoctaciones bueno pues no porque en algunos otros sitios están recaudando además de por pernoctaciones por cruceros

en otros sitios están hablando ya de recargo para las viviendas turísticas como

que hay variantes en lo que puede ser cómo recaudar ese impuesto y a través de qué figura

lo pongo dicho y hecho y todos los ayuntamientos a recaudar como locos pues no pues no y es muy importante

absolutamente fundamental porque si no no tendremos ni sabremos cuántas pernoctaciones se han realizado cuántos cruceristas han venido cuántas viviendas turísticas

complicidad y buscar la complicidad de todos esos agentes más allá del puro voluntarismo que yo entiendo en la propuesta de podemos yo no he tachado

decía que no se trata de una cuestión de que el consejero se cuelgue una medalla porque vaya más adelante que otros consejeros y diga en euskadi vamos a poner una tasa no se trata de eso

de hacer un debate y una reflexión y cuando los sectores concernidos digan exactamente queremos una tasa

y entonces podremos circunscribir el debate a quién cómo y cuándo se recauda esa tasa eso es lo que veníamos a decir y me he debido expresar muy mal en mi primera intervención

señor casanova en el orden del día de la sesión de hoy en el punto ocho tenemos una discusión sobre una proposición no de ley sobre el tema

quién tiene y quién no tiene el liderazgo y lo comprobaremos por lo tanto ahora no entro y lo dejo para el punto ocho eta

el pnv es favorable a permitir y a posibilitar la implantación de una tasa turística

el partido socialista es necesario primero que se reflexione conjuntamente con los municipios a través de eudel y con el sector

señorías en la interpelación que presentábamos en el mes de junio al señor consejero de medioambiente política territorial y vivienda hacíamos referencia a la ley aprobada

y le preguntábamos primero por el desarrollo reglamentario que requiere esta ley a lo que se nos contestó que bueno que estaban en ello que estaban en tramitación del decreto y en segundo lugar nos decían bueno que en ese tránsito

cuyo contenido se incorporará posteriormente al decreto evitando así cualquier vacío legal

administrados pero en la interpelación también le poníamos de manifiesto las quejas que nos han llegado

empresariales desde sindicatos promotores de actividades para desarrollar en los polígonos industriales de la comunidad autónoma vasca y otros agentes que se quejaban de la tardanza y demora en responder y dar salida

empresas que llaman manifestando la impotencia ante la no respuesta de la administración le preguntábamos

y tardanza en la respuesta a los expedientes de solicitudes sobre suelos contaminados nos decía el señor consejero que la cifra promedio de entrada de expedientes en el área de suelos contaminados desde enero de dos mil diecisiete asciende a setenta y cinco expedientes mensuales

se situaba entre treinta y cincuenta expedientes mensuales es decir casi se ha duplicado el número de expedientes mensuales que hay que atender en el área de suelos contaminados en la réplica

rápida al administrado y no generarle problemas por la incapacidad de la administración

le preguntábamos qué medidas iba a tomar a lo que el señor consejero decía que la ley preveía trece puestos de trabajo para atender este servicio y estas nuevos tipo de expedientes y que necesitaba ocho más para poder atender completamente el servicio y

pero el señor consejero me hizo trampa porque lo que no dijo el señor consejero

tramitación de estos expedientes los hace a través de ihobe con una asignación económica para que ihobe contrate empresas o sea que aquí el gobierno de españa ha tenido poco de influencia a la hora de dinamizar la gestión de estos expedientes señor consejero y esa

a esta gestión de los expedientes pues lejos de subir se ha reducido por lo tanto

y el acuerdo que hemos llegado con el grupo de elkarrekin podemos que ha presentado una enmienda y que nos ha parecido oportuna

socialista y el grupo nacionalistas vascos que no sé por qué no han firmado la enmienda de transacción porque de alguna manera su iniciativa viene recogida en la enmienda de transacción pero bueno no voy a entrar creo que van a votar a favor o si no ya lo dirán en cualquier caso creo que estamos en la misma onda

la enmienda que hemos llegado de transacción por un lado y me ha gustado la aportación de podemos en el sentido de considerar que el trabajo contra la contaminación del suelo es un reto de primer orden

sino también por sus implicaciones para la regeneración urbanística y económica de nuestros pueblos y ciudades es decir no estamos ante una mera tramitación si no que

desde el desarrollo de la ley desde la aplicación de la ley y normas que inciden en la contaminación de los suelos es proteger los suelos generar suelos

han sufrido contaminación y mejorar el territorio y esa es una labor muy importante porque la contaminación se queda ahí permanente y si no hacemos labores de recuperación difícilmente vamos a conseguir una mejora por lo tanto

y asumamos la conciencia de lo necesario que es el tratar los suelos en mantener y recuperar los suelos contaminados y esa es una labor muy importante y para eso

medios técnicos medios técnicos desde empresas que se contraten porque

hace falta un grado de técnica que igual la administración no lo puede tener y que se contrate fuera y por otra parte medios personales para

también décimos en el punto dos que el parlamento insta al gobierno vasco a que en la elaboración de los presupuestos para dos mil dieciocho comprometa los recursos económicos materiales

con el fin de que el gobierno pueda dar una adecuada respuesta en tiempo y forma a los expedientes sobre suelos contaminados tramitados como consecuencia de la promulgación de la citada ley

de desarrollo y también décimos que el parlamento insta al gobierno vasco a que establezca un procedimiento público para organizar la gestión de los expedientes derivados de la aplicación de esta ley con objeto de evitar retrasos injustificados en sus resoluciones yo creo que hay que

un ciudadano va con un expediente a una oficina de administración tiene que saber

o ir comunicándole cómo va su expediente porque hoy por hoy puedo asegurarle que hay bastantes proyectos

por lo tanto creo que esto hay que mejorarlo más que nada para que

y qué trámite está llevando y en qué fase se encuentra el expediente y como tenemos un acuerdo yo no voy a entrar en debate con nada creo que nos alegramos muchísimo de este acuerdo que yo creo que puede ser

mayoritario en la cámara y entonces lo que nos queda es tener unos presupuestos potentes para que su departamento pueda desarrollar todas esas funciones

egun on guztioi la cuestión de la contaminación del suelo surge hace

debido a la repercusión de ciertos casos internacionales y a que después de la crisis

euskadi se puebla de ruinas de cientos de ruinas industriales que

pueden dar lugar a procesos de contaminación del suelo y hay que decir que aquí en euskadi

reaccionan de una forma positiva se produce una conjunción de factores en euskadi por un lado el liderazgo institucional

y la aparición la existencia de un colectivo de profesionales de alta valía y cualificación que en ese momento están preparados para hacer frente al problema

por un lado un consenso institucional que propicia

la existencia o la dedicación de medios humanos materiales y económicos suficientes que propicia la formación de grupos interindisciplinares de trabajo toda esta política tiene como resultado

en segundo lugar que se diseñen herramientas de actuación a través de unas guías técnicas y metodológicas

posibilitan diagnosticar evaluar y corregir los problemas de contaminación del suelo en tercer lugar que se prioricen las respuestas a través de un plan director de la calidad del suelo en cuarto lugar que se financien las actuaciones y en quinto lugar que se prevenga la aparición de nuevos casos a través de

en ese momento euskadi era modelo no solamente en el estado sino en

pero veinticinco años después varios de esos factores han desaparecido por un lado ya no existe el liderazgo político institucional que había

la escasez de medios que nos ha provocado la crisis y otros factores así el presupuesto al que se refería la señora lópez de ocariz de la sociedad pública ihobe para la gestión

directamente de la mitad cuando el número de expedientes entre dos mil diez y dos mil dieciséis prácticamente se ha incrementado un cincuenta por ciento por otro lado ya no hay

el problema ya no existe o bien de que está encauzado y nada más lejos de la realidad el último inventario de suelos potencialmente contaminados

que tiene euskadi afectadas por este problema prácticamente el dieciséis por ciento

afectado ha podido sufrir de un proceso de contaminación del suelo puede estar potencialmente

por lo tanto tenemos un problema que continúa a día de hoy un problema que continúa y que supone dos tipos de riesgos uno un riesgo para la salud de las personas es ya

hay otras cuestiones como los disolventes clorados los metales pesados el amianto y otros contaminantes muchos de ellos cancerígenos que están y pueden estar en muchas de esas parcelas de esas doce mil quinientos parcelas que todavía están inventariadas eso puede provocar la contaminación

para usos humanos de cauces de ríos de parques públicos de espacios de juegos infantiles

y es un problema que sigue manteniéndose por otro lado tenemos un riesgo para el desarrollo de las propias actividades humanas y por ende de la economía porque esas parcelas que todavía están inventariadas que están hipotecadas por ese pasillo ambiental impiden el desarrollo urbanístico o dificulta el desarrollo urbanístico de muchas ciudades de muchos pueblos y por lo tanto obligan a esos pueblos y a esas ciudades a colonizar nuevos suelos suelos naturales

en lo cual es una gestión irresponsable de un patrimonio escaso que hay en euskadi como es el suelo desde elkarrekin podemos

era la oportunidad de dar un golpe de timón a la situación actual en la que se encuentra la política de protección del suelo en euskadi y por lo tanto presentamos una enmienda

que son las que hemos consensuado con el grupo popular en primer lugar reconocer de nuevo veinticinco años después que el problema de la contaminación del suelo sigue siendo una prioridad de país sigue siendo un reto social y medio ambiental de primer orden en segundo lugar que

para el presupuesto de dos mil dieciocho se le dedique a esta cuestión los recursos materiales humanos y económicos adecuados

llevar a cabo la labor del gobierno y en tercer lugar que se habilite un procedimiento público para gestionar los expedientes pendientes porque como ha dicho la señora lópez de ocariz están dado lugar a motivo de conflicto y entendemos que en aras de la transparencia que promulga este gobierno la transparencia en la gestión la transparencia y en la información es necesario habilitar un procedimiento que regule toda esa actividad de manera que se eviten todos estos conflictos de intereses entendemos que estas tres medidas que hemos consensuado con el grupo popular deberían de ser del apoyo de toda la cámara no por las medias en sí sino porque como he explicado esto debe ser un reto de país que

de la confrontación política evidentemente se podría achacar muchas cuestiones a los gobiernos que

ahora mismo de centrarse en eso sino de retomar ese impulso que hubo y de conseguir que este problema deje de serlo y pase a ser de nuevo un reto
de país dirigido a las soluciones nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

presidenta y buenos días casi buenas tardes ya a todos efectivamente la señora lópez de ocariz nos trae una iniciativa hoy a este pleno sobre un tema del que ya

iniciativas en sus diferentes formas preguntas la legislatura pasada solicitudes de información que culminan con la interpelación al señor arriola hace

efectivamente es un tema pendiente la ley la ley que tiene que ver con la contaminación del suelo fue aprobada por unanimidad

no fue demasiado difícil llegar al acuerdo para la aprobación de ese proyecto de ley puesto que todos los grupos parlamentarios que participamos en aquella ponencia entendíamos que era algo que había que hacer euskadi tiene un tejido industrial que ha marcado también la situación de sus suelos y efectivamente

como aquí se ha dicho los expedientes no dejan de llegar a la administración pública vasca es verdad que cada vez son más y la demanda para poder solventar esa situación necesitan de una actuación clara por parte en este caso del departamento que lidera el señor arriola la disposición quinta adicional de este proyecto de ley

que es ahí el núcleo central de lo que hoy el partido popular nos traía

usted sabe que votaremos a favor de la enmienda que usted ha acordado

porque como le digo creo que hoy no es tanto el debate de qué es el contenido real

sino cómo se hace todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlo y por tanto yo no me extenderé en explicar cómo se ha llegado a esa situación cómo es la situación actual

todos solución al comienzo de esta legislatura la elaboración de esta estrategia estaba justo empezada este gobierno llega en diciembre es cuando el señor urkullu nombra a los consejeros

esta estrategia que quizás tendría que haber empezado antes pues seguramente usted sabe igual que yo que es muy complicada esa estrategia que es mucho más que ponerse a trabajar para el desarrollo de esta ley

y el departamento del señor arriola está trabajando en ello debemos reformular las prioridades de la planificación también en este caso y es importante marcar plazos marcar plazos que ya hemos venido hablando los diferentes grupos parlamentarios pero entendemos que deben ser plazos reales porque luego es cuando llegan los incumplimientos

por eso entendíamos bueno pues que hay que hablar de cosas claras y razonables por qué no hemos firmado la enmienda pues algo tan fácil como porque estaba registrada antes de poderla casi usted sabe llegar a un acuerdo final ese es el motivo pero desde luego

estar de acuerdo con lo que ustedes planteaban es verdad que nosotros entendíamos que quizás hubiera sido más acertada poner se valorará la posibilidad de incrementar ustedes saben igual que yo cómo luego es la negociación presupuestaria y ustedes saben que no solo depende los partidos que conformamos el gobierno sino que ustedes tienen mucho que decir en eso

mayor de la que se ha tenido en los ejercicios presupuestarios anteriores pero ustedes también sabrán que cuando llegue la hora de negociar a ver si es verdad que lo marcan como prioridad y a ver si es verdad que el señor arriola le da la partida presupuestaria

el grupo parlamentario socialista por lo tanto la ley fue acordada por unanimidad hoy la enmienda parece que será acordada por unanimidad

el grupo parlamentario socialista y el departamento que lidera el señor arriola reconoce la necesidad de avanzar en esto sabe que el suelo de la comunidad autónoma vasca

y es la hora de poder aprovechar esos suelos para poder continuar construyendo país porque a veces nos empeñamos en instaurar

por tanto felicitarnos del acuerdo confiar seguro que el gobierno va a cumplir
el mandato que esa disposición quinta adicional dice y les esperaremos en la negociación presupuestaria para que ustedes también cumplan lo que dicen que es tan importante nada más muchas gracias eskerrik asko

legea aho batez onartu zen hubo unanimidad para la aprobación

prevención y corrección de la contaminación del suelo por eso yo creo que

de los treinta años últimos una vez de reconocer que después de una fuerte

era necesario poner límite a esa contaminación del suelo

comentar que la ley del dos mil quince tiene como premisa principal la de simplificar las cargas administrativas y mantener los estándares de calidad en euskadi

que esta ley mediante la clasificación de las actividades en función de su potencial de contaminación disminuye la intervención de la administración al mismo tiempo que garantiza la transparencia la eficiencia la economía y la eficacia de las actuaciones

administrativos ligados a la calidad del suelo y algo muy importante se establece el principio de no tutela

para la tramitación volver a recordar que euskadi ha sido pionera en afrontar responsablemente el problema de suelo contaminados

pero recordar también que en aquellos años ni había herramientas ni conocimiento técnico para actuar y saber cómo teníamos que corregir

y la causa de la moción es que esta ley prevé un desarrollo reglamentario posterior para la sistematización de los instrumentos necesarios para conocer y controlar la calidad de ese suelo

el consejero de medio ambiente el señor arriola culminará con la aprobación del decreto de desarrollo de esta ley la ley cuatro barra dos mil quince creemos que esta normativa por su especial transcendencia

y entendemos que después de dos años de aprobarse la ley pues hay un tiempo

para ver qué temas

hay que mejorar y en este sentido cuando la señora lópez de ocariz preguntó

por este decreto de desarrollo de normativas que tiene que llevarse a cabo

que el sailburu del ramo nos dijo que

para finales de este año era el plazo que más o menos se habían marcado a la aprobación de la ley para el desarrollo del decreto

a la queja ha ampliado los promotores de actividades que

un retraso en la tardanza de las salidas de la resolución de esos expedientes de los suelos

de expedientes en el área de suelos contaminados desde enero de este ha venido aumentando lo cual es un buen indicador puesto que nos da cuenta de una reactivación de la economía de la actividad económica y de la generación de empleo bueno con esta

que se propone que como ha dicho

la portavoz del grupo socialista no ha sido no

ya que nosotros teníamos una previa que nos parecía

vamos a votar favorablemente para que se valoren todas las necesidades

y de los instrumentos de desarrollo para que

que vayan entrando y los que están en necesidad de salida y bueno volver a resaltar que

decía el señor de elkarrekin podemos decía

en otros tiempos que el impulso sobre la resolución del problema de los suelos

ha habido un mayor impulso bueno en cada época

se han dado unas circunstancias diferentes y en aras

recopilatorio de las normativas aprobadas en este parlamento y ya desde los años noventa desde que detectamos que hay un problema

el gobierno se pone manos a la obra en la resolución y adaptación

para ir solucionando estos problemas creo que todos los grupos estamos sensibilizados

de hecho la ley cuatro barra dos mil quince se aprobó por unanimidad

datos de que todos estamos a favor de que se lleven adelante los procedimientos y como nos adelantó el consejero el gobierno está trabajando en ello y creemos que la negociación de los

momento donde debemos de plasmar las necesidades derivadas de esta ley

y decir que votaremos positivamente a la enmienda

eta gero esaten denean atender a los expedientes teniendo en cuenta el orden de registro de entrada ere ez zaigu iruditzen prozedura oso baliagarria denik

de más dinero los presupuestos son los que son urako zuzendari berria ernesto

invertir más y arreglar esto mejor urako martínez de cabredo etorri zenean berdina esan zidan ya me gustaría a mí

berdina esan zenion qué más me gustaría a mí que tener mayor plantilla klaro hau ez da

gero pertsonalaren inguruan ez zegoen aipamenik medios técnicos o lo que sea

erantzuteko txandan parte hartu behar du bai lópez de ocariz anderea sí señora presidenta si me lo permite desde el escaño

becerra porque creo que ha sido muy importante

tanto el señor otero como la señora rojo o la señora betolaza por lo tanto es un acuerdo mayoritario y que se tiene que reflejar en los presupuestos
y sin más agradeceros las aportaciones nada más muchas gracias eskerrik asko

dela aurrekontuan tengo que decir a la señora rojo que

en el que tenemos ahora mismo vigente elkarrekin podemos hizo varias enmiendas para incrementar el presupuesto de medio ambiente y fueron ustedes los que tumbaron con sus votos por lo tanto por nuestra parte siempre ha tenido esa prioridad tendrán que

del socio mayoritario del gobierno no es problema del elkarrekin podemos sino del partido socialista

gracias presidenta la verdad que no iba a intervenir pero esto de que cuando hay unanimidad

así acabamos la comisión de ayer también con unanimidad que no me importa eh que bajo encantada le diré

yo creo que yo bajo aquí y usted me ve y desconecta he dicho que se aprobó una ley que había que desarrollar una estrategia

hace falta más dinero para que esto se pueda llevar a cabo eso he dicho no se hacen tan bien las cosas sino quedan cosas pendientes es lo que he dicho

porque ella es la oposición nosotros somos el gobierno por eso la iniciativa no ha venido del partido socialista

suele ser lo normal entonces ella trae una iniciativa parlamentaria nosotros analizamos la iniciativa y décimos

para poder realizarlo porque claro está muy bien esto de

dinero es que no se puede llevar a cabo entonces por eso nosotros y además he reconocido preferíamos que pusiera valoraremos la posibilidad de

inteligentemente como partidos de la oposición han planteado para intentar presionar aquí sí al partido del gobierno para llegar a un acuerdo

hay una iniciativa y nosotros tenemos que presentar una enmienda para poder negociar

esto es el gobierno tiene que ver lo que es capaz de poder llevar a cabo que hay mucho más detrás

hay que ver cómo se puede desarrollar hay que ver qué nivel de trabajo hay y entonces usted decía

señor arriola el señor director de ura decían ya me gustaría a mí y a usted señor otero no le gustaría

y al señor retortillo le gustaría al señor darpón le gustaría si usted va preguntando a todos los departamentos todos necesitarían o entienden que necesitan tener más dinero para desarrollar las políticas que quieren llevar a cabo

y entonces no se trata de ejercer presión se trata de comprometerse para ser capaces de desarrollar unas políticas concretas ni es la caja de los deseos

el saco sin fondo es que hay un dinero concreto y por eso he dicho también en mi primera intervención vea usted como no me escucha que hay que marcar las prioridades

la preparación de un documento técnico de bases de trabajo porque entendía que a partir de ahí era como podía empezar a desarrollar lo siguiente

ese decreto que le explicó a ustedes el día de la interpelación se han hecho cosas queda por hacer claro y es necesario una partida presupuestaria para poder concluir los trabajos y dicho esto iré como también he dicho en mi primera intervención que va a llegar la hora de negociar los presupuestos

y entonces está muy bien esto de para nosotros es fundamental

para la salud para todo esto que nos suelen decir que yo lo comparto en la filosofía general luego ya si bajamos al detalle ya otra cosa sería pero es que luego hay que sentarse con el partido del gobierno a negociar y ustedes son el no por el no

es que está muy bien yo comparto con usted lo que viene a decir no podemos decir que nosotros autocomplacencia porque no es cierto

es más contundente y era más fácil negociar y más real lo que nosotros proponíamos que

esto va a salir por unanimidad como salió la ley la enmienda se presenta porque es una forma de negociar políticamente el presupuesto como

bienvenido sea en la negociación pero no se puede exigir y exigir para luego no comprometerse

que es lo que ustedes suelen hacer cuando llega la hora de votación de los presupuestos por lo tanto el gobierno vasco no tiene un arca de sacos sin fondo el dinero es finito hay que priorizar y aquí se han empezado a hacer las cosas hay una ley

en eso está el departamento del señor arriola y en eso está el gobierno al que ustedes intentan ver cosas que no existen nada más muchas gracias eskerrik asko rojo

en realidad no voy a entrar en una discusión no me parece que lo suyo sea entrar a una discusión

yo desde luego mi intención sincera

la cartera de medio ambiente a la hora de la negociación presupuestaria y que

que tiene que aumentar en todo caso no sé si no se ha entendido pero lo digo más explícitamente por si acaso y para cerrar lo que

no es infinita pero es que estoy dando números de caja precisamente estoy diciendo que en el año dos mil diez

ciento treinta millónes para medio ambiente y sobre un presupuesto de once mil cincuenta y nueve millónes de euros es decir con una caja más grande tenemos setenta millónes de euros para este año

entonces no es suficiente con decir que el dinero es finito o es infinito hablamos de prioridades pues si estamos hablando de prioridades yo lo que estoy diciendo es que los presupuestos para el medio ambiente han bajado de prioridad han bajado de nivel están en una

de categoría y que ustedes están no para decir ya me gustaría tener más dinero

dentro de la coalición de gobierno para conseguirlo eso es todo eskerrik asko otero

gracias presidenta consejera consejero

desde luego vamos a anunciar el voto en contra por parte de nuestro grupo a la proposición de ley que se plantea la enmienda a la totalidad en una proposición de ley es el voto en contra en este turno parlamentario porque está claro

ideológica la que nos impide lógicamente apoyar el trámite

parlamentario al cauce legislativo y desde luego que compartimos en este caso el criterio del gobierno yo creo que ha hecho en pocas líneas

en pocas líneas ha dicho algo que efectivamente analiza y define lo que pasa con esta iniciativa desfiguración de la institución de los consejos escolares por la propuesta de tal manera que la dejaría irreconocible en términos de derecho comparado y probablemente completamente ineficaz para su fin de que se vulneraría la legislación orgánica de la discriminación que se pretende al excluir sectores sociales afectados de la participación en el foro es un argumento inequívoco para votar en contra de cualquier iniciativa que plantee estas cuestiones de desfiguración de un trabajo

acomodo al derecho comparado y sobre todo de discriminación de elementos y de sectores sociales claves

claves en el desarrollo de nuestra sociedad nos hemos opuesto a esta reforma ya que no estamos de acuerdo con el contenido y fondo de la misma la señora ubera tiene que entender perfectamente que nosotros no opongamos a esta reforma que ella plantea yo creo que lo ha hecho precisamente sabiendo que nos íbamos a oponer a esta reforma

sino que destruye representatividad y objetividad en el consejo escolar de euskadi y en los consejos territoriales por alguna incomprensible limitación que hace que no podemos entenderla desde luego no podemos asumirla en cualquier caso pero ni siquiera como elemento

ese cercenamiento a esa limitación que hace su iniciativa además vemos en algunas de las propuestas dificultades jurídicas graves que podrían ser impugnadas pues eso sería otra cuestión pero efectivamente

nosotros por otro lado no hemos detectado que exista la necesidad de modificación de esa ley en el sentido que eh bildu plantea y por eso en esas claves no hemos detectado necesidades

en alguna iniciativa nuestra una proposición de ley también que mi grupo presentó y que ahora está en trámite en la inclusión de representantes de la economía social de las cooperativas de enseñanza en los consejos escolares esa parece que se va a discutir con algunas aportaciones que hacen otros grupos parlamentarios en relación con el consejo escolar y aprovechando la reforma y de forma ordenada y conforme al reglamento pues va a ver un debate yo creo que va a ser interesante y que sí que va a ser

no tiene sentido señora ubera ese afán publificador e intervencionista y la obsesión con hacer desaparecer la iniciativa privada de todos los sectores en este caso de la educación

que forman parte de iniciativas privadas en niveles y en ámbitos de representación

representantes sociales que juegan un papel empresariales patronales en generación de puestos de trabajo en generación de oferta educativa pedagógico lingüística en la enseñanza de qué sirve

esa obsesión votaremos en contra desde luego ha hablado de que puede haber alguna mejora técnica esto no es una mejora técnica

ideológica que nosotros no compartimos nosotros queremos reforzar la enseñanza pública pero también queremos reforzar la enseñanza concertada

o la ligada a la economía social y eso desde luego no ocurre en ningún caso con el planteamiento de la iniciativa tenemos desde luego

en la educación tenemos graves déficits en educación pero señora ubera su iniciativa aumentaría esos déficits y los problemas de la educación muchas gracias

de la proposición de ley formulada por el grupo parlamentario de euskal herria bildu relativo a la modificación de la ley trece barra ochenta y ocho de veintiocho de octubre de consejos escolares de euskadi y si no recuerdo mal el seis de abril hace escasos meses se tomó en consideración en la sesión plenaria de ese mismo día

relativa a la modificación de esa misma ley que recuerdo se aprobó por unanimidad en esta cámara en la que el grupo de euskal herria bildu está incluido

tratamos exactamente el mismo asunto que tratamos hoy presentado por distintos grupos parlamentarios en esa sesión el grupo popular presentó una iniciativa de modificación de la ley

las cooperativas de enseñanza no estaban representadas no forman parte en la ley de consejos escolares que estamos tratando y a nuestro grupo incorporar la representación de las cooperativas de enseñanza nos pareció una mejora sustancial puesto que ayuda a enriquecer los propios consejos escolares

hay otros sectores que podrían haber estado incluidos en aquella propuesta

también hay que tener en cuenta que en euskadi hay muchas cooperativas de enseñanza que suponen un porcentaje enorme de nuestro sistema educativo como para que tuvieran representación

puesto que el consejo escolar se constituyó como un órgano consultivo de participación precisamente

para que todos los sectores de la comunidad educativa puedan contribuir para que tengan voz y para que sus aportaciones mejoren el sistema educativo

y por ello los grupos parlamentarios de esta cámara presentamos enmiendas parciales cosa que podían haber hecho también ustedes hicimos aportaciones mediante las enmiendas a la proposición de ley

una insuficiencia de representatividad de algunos agentes educativos por ello hicimos en aquel momento las modificaciones que considerábamos oportunas y que se discutirán

porque debe regular el derecho a la participación y a la responsabilidad de las distintas piezas del sistema educativo pero son enmiendas todas ellas que se presentaron a la proposición de ley presentada entonces por el grupo popular que presentamos todos los grupos de esta cámara

de consejos escolares no entendemos por qué después de aprobar por unanimidad la toma en consideración de aquella proposición y después de presentar enmiendas a la modificación de esta

me reconocerá que es como poco sorprendente y como he dicho como solo puede haber una ley de consejos escolares de euskadi hemos votado en contra de la toma en consideración de esta nueva

para que el actual consejo gane en eficiencia y en eficacia como así reconoció la propia actual presidenta del consejo escolar

reconoció que había margen para mejorar para exigir más implicación de los actuales componentes del consejo y también para presentar ese informe de evaluación anual

eguerdi on antes de comenzar mi intervención me gustaría manifestar nuestro dolor nuestra repulsa y nuestra condena ante el asesinato de una mujer en la localidad

nuestra condena y nuestra repulsa a todas las violencias machistas las que se ven las que no se ven y a todas y cada una de sus manifestaciones producto sin ningún lugar

y mujeres volviendo al tema

es un tema que genera interés que genera inquietud con la propuesta

a favor y de la propuesta que ha hecho euskal herria bildu y que también hemos votado a favor

sus aciertos y sus errores pero que se merecía debatirse en una ponencia y aquí sí que

entre estas nueve líneas que el gobierno vasco se ha currado para decir que no y la intervención del señor urrutia pues me han animado a decir

dejaría irreconocible no señala en qué que dice que en términos de derecho comparado sería irreconocible y probablemente ineficaz señálenlo señor urrutia usted ha explicado un poco más pero el gobierno

pero con el gobierno sí entonces que se vulnerarían

del dictamen del gobierno no entendemos nos parece un dictamen pobre y por eso también hemos en contraposición a eso ya que nos parece que la

y puede ser debatida en una ponencia pues por eso hemos votado a favor

las propuestas que nos gustaría hacer y que seguiremos haciendo

no se pueda explicar en el sentido amplio de lo que quería hacer yo en este momento para esa ponencia y que algunas de ellas están recogidas en la propuesta que hacía

de los consejos municipales también porque nos parece muy importante tanto que en el congreso otros partidos también votan

en los parlamentos nos parce que esa es una propuesta interesante de estudiar nos parece que por ejemplo

muchas más y también podemos incluirlas y porque nos parece que nunca votamos vamos a votar a favor y como no puedo explicar todo

a favor de eso de esta propuesta de euskal herria bildu porque pensamos que no podemos cercenar ningún espacio de debate en el que podamos plantear los modelos de enseñanza los modelos de gestión

a pesar de algunos hay más modelos de país hay más modelos de enseñanza y a pesar de algunos hay euskadi hay mucha euskadi más allá de ellos y de ellas eskerrik asko